plana osatzen duten zerbitzu guztiekin batera la ley de policía vasca en vigor aprobada en julio de mil novecientos noventa y dos permitió en su origen y ha permitido con las cuatro modificaciones de las que ha sido objeto en el trascurso del tiempo

el desarrollo del modelo policial vigente y también de los servicios policiales que nos garantizan un modelo que cuenta con dos pilares

y las policías locales con sus propias competencias cada cual desde su autonomía son dos policías que se complementan y que están plenamente integradas en el conjunto de los servicios del plan general de seguridad de euskadi ambos policía

tienen hoy un elevado nivel de reconocimiento social y la confianza de la ciudadanía en la valoración de los servicios que ofrecen a ese nivel de confianza y valoración positiva

decisivamente el firme y continuado impulso político tanto del gobierno vasco como de los municipios y sobre todo fundamentalmente

la manera de entender en cada momento las necesidades de seguridad pública de nuestra sociedad son los cambios sociales las nuevas demandas en materia de seguridad la que hacen necesaria la modificación

proximidad conocimiento cercano de la sociedad a la que sirven compromiso con los valores de la ciudadanía vasca trabajo coordinado y eficacia policial son hoy señas de identidad de nuestro modelo policial una policía

implicada en una sociedad abierta plural bilingüe constituida por ciudadanas y ciudadanos iguales en derechos gurea bezalako

que hoy proponemos con este proyecto de ley de quinta modificación de la ley de policía vasca

y también de las policías locales en estos momentos la academia vasca de policía y emergencias cuenta con alrededor de seiscientos alumnos y alumnas aspirantes a policías locales o ertzainas para finales de

de mil con este proyecto de modificación de la ley de policía vasca tenemos una clara oportunidad de ofrecerles a estas nuevas generaciones un marco legal renovado y actualizado acorde al desarrollo profesional en las funciones que asumen y con el objetivo de mejorar su desempeño

prácticamente su literalidad con el que presentamos en la anterior legislatura ya entonces en su proceso de elaboración fue objeto de numerosas aportaciones y alegaciones sobre todo por parte de los municipios integrados en eudel y también por parte de los sindicatos de la ertzaintza y los policías locales erne esan ccoo que a pesar de los retrasos sufridos no han dejado de reclamar su aprobación como bien han podido escucharles en las comparecencias parlamentarias y también en declaraciones públicas más recientes también fue objeto de aportaciones por parte de la asociación

de jefes de policía local de euskadi todos ellos han expresado de forma reiterada la necesidad de modificar esta ley mantienen

legea gaurkotzeko aukera honek huts egitea voy a tratar de resumirles de la manera

aquellos aspectos que considero más relevantes en esta modificación que hoy presentamos hablaré de los cambios que en el proyecto de ley refuerzan el actual modelo policial me referiré a la modificación de aspectos organizativos y administrativos de mejora

trataré también de cuestiones relacionadas con la selección e ingreso en los cuerpos de policía vasca también de las medidas que impulsan la igualdad

funciones policiales sobre el modelo policial

del contenido del código europeo de ética de policía el código ético europeo fija las pautas de comportamiento del personal policial y de las autoridades policiales en su relación con la ciudadanía y también en las relaciones internas en la propia organización pautas de comportamiento

a la transparencia a la rendición de cuentas y a la participación activa en las políticas de seguridad pública en este sentido quiero destacar la creación de una comisión de control y trasparencia de la policía del país vasco se trata de un organismo que con carácter

funcional respecto a la institución policial a la que representa estará compuesto por personas expertas incluyendo expertos policiales externos su función es analizar a petición de los órganos competentes conductas o prácticas que han motivado quejas y que inciden de forma negativa en la confianza de la ciudadanía

o de un operativo o bien durante la custodia policial hubieran tenido el resultado de lesiones o fallecimiento de una persona

preserva en todo caso la neutralidad e independencia de quienes la forman el proyecto de modificación de la

también contempla como novedad mecanismos de evaluación mejora y refuerzo del sistema de estímulos al buen hacer policial mecanismos de evaluación

algunos complementos como el de productividad complementos de carrera profesional vinculados a la evaluación del desempeño otra de las reformas propuestas

la carrera profesional horizontal en la ertzaintza lo que implica la instalación de un mecanismo de reconocimiento que permite

en materia de promoción interna se favorece la carrera administrativa la carrera profesional en vertical minorando el número de años exigidos para

se suprime el límite máximo de tres convocatorias que en la formulación actual impide seguir participando en los procedimientos de promoción interna

eliminación porque la disposición actual cercena el derecho a la carrera administrativa a aquellos que incluso habiendo aprobado las pruebas en el curso de

se admite la promoción interna la asistencia

interna a quienes estén en situaciones administrativas asimilables al servicio activo como es excedencia por cuidado de hijos o hijas

excedencia por violencia de género y otros servicios especiales lege proiektuan

garantizatzeko neurriak ere finkatzen dira destacan por novedosas las medidas de acción positiva a favor de las mujeres en procedimientos selectivos por turno libre siempre de un modo compatible con los parámetros exigibles

comunitaria de previsión legal proporcionalidad y razonabilidad con estas y otras medidas de acción positiva para el acceso

se pretende corregir el desequilibrio hoy existente algo que paso a paso vamos observando en la incorporación de las nuevas promociones a la ertzaintza donde

algo que con la nueva propuesta recibirá un impulso importante y absolutamente necesario porque la realidad hoy es bien distinta el porcentaje de mujeres en policía local no alcanza el doce por ciento

que he comentado en definitiva lo que este proyecto de ley posibilita es la elaboración de planes específicos para corregir situaciones patentes de desigualdad y en favor de la igualdad de oportunidades

entre las modificaciones de carácter organizativo y administrativo que conlleva esta redacción

destaco por un lado el servicio activo modulado que aunque en el caso de la

en el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo con la aprobación de este proyecto de ley el servicio activo modulado el que posibilita seguir en activo

aplicable a policías locales por tanto también las policías locales disfrutarán de la posibilidad de un régimen de jornadas sin turno de noche y en todo caso con una reducción de la

también se recoge en el proyecto de ley la regulación de la situación administrativa de segunda actividad por insuficiencia

aquella que pone límites para el desempeño ordinario de las tareas policiales que tienen asignadas en la nueva regulación esta situación administrativa no está sujeta a la edad sino que se vincula directamente

psicofísicas reales del funcionario o la funcionaria así quien tuviera derecho a una segunda actividad permanecería en activo trabajando siempre que este permitiera una segunda actividad o de lo contrario pasaría a otro puesto más acorde con sus condiciones en cuanto

al régimen de derechos y deberes de ertzainas y policías locales

o discapacidad la aplicación de estos derechos ya no se vincula necesariamente al comportamiento meritorio del o la agente policial otro de los aspectos que aborda este proyecto de ley tiene que ver con el régimen disciplinario se trata de establecer mecanismos internos eficaces

más allá de la mera investigación de casos particulares de indisciplina y permitan patrones y factores de riesgo con la finalidad

en los procedimientos de trabajo o en el cuidado del clima laboral es importante como digo analizar esos patrones y esos factores de riesgo en este sentido el régimen disciplinario se aproxima más al régimen general de la administración pública ofreciendo más garantías

expedientados o expedientadas en el apartado disciplinario en la calificación de faltas muy graves se introduce también el de acoso sexual y sexista y el acoso laboral reiterado

de videocámaras policiales para el régimen sancionador en el texto modificado entre otras medidas se propone tener en cuenta el historial profesional como atenuante

en el apartado que se refiere específicamente a la policía local se consolida jurídicamente la posibilidad de actuar fuera del término municipal al que pertenecen para el ejercicio de funciones muy concretas sobre la estructura policial de los

así las categorías correspondientes a la jefatura de los cuerpos de policía local se estructuraran en función de la población

integren cada cuerpo para las poblaciones o municipios que no cuenten con policía local se

de regular la circulación en núcleos o áreas urbanas el carácter de servicios policiales que complementa la

en tres aspectos que son claves en primer lugar la autonomía organizativa y funcional de cada policía en segundo lugar

en segundo lugar la coordinación y colaboración permanente para evitar duplicidades

y en tercer lugar los procesos de selección y formación en los que hoy más que nunca hay que aunar esfuerzos compartir criterios experiencia métodos y conocimiento

academia vasca de policía y emergencias se constituye como un órgano permanente de selección y especialización en los procesos selectivos tanto de

una realidad que de hecho ya se está consolidando en breve vamos a publicar las bases para la tercera convocatoria unificadas de policías locales

gerotan uztea el proyecto de la ley de policía vasca

momentu bat es una oportunidad para reforzar el modelo policial que queremos para euskadi

de servicios de la ciudadanía a los nuevos retos de seguridad una modificación de la ley actual necesaria y oportuna para que

de referencia actualizada invito por tanto a todos los grupos parlamentarios a abrir el debate

aquellos aspectos matices y propuestas que puedan mejorar el texto presentado

tiene una vocación clara consolidar el presente y fijar unas bases sólidas para el futuro de la policía vasca eskerrik asko eskerrik asko

controvertido y un tema complejo para cualquier estado de derecho para cualquier democracia en cualquier lugar del mundo y por supuesto aquí también

pero también al día a día de ciudadanos y ciudadanas de nuestros municipios

debates profundos y debates estratégicos sin embargo después de diez años metida en un cajón el gobierno decidió traernos al parlamento este proyecto de ley siendo muy conscientes de que su debate se iba a dar en tiempos preelectorales municipales

y todas sabemos que el tiempo preelectoral no es adecuado para el debate sosegado en temas estratégicos y sensibles y además creo que lo hemos comprobado hace bien poco para mí eso es una irresponsabilidad política para con la ciudadanía esto no se hace cuando hay realmente voluntad política para alcanzar acuerdos amplios y transversales

eta hirugarrenik gobernu hau gutxiengoan dagoelako y para este proyecto de ley el gobierno no ha hecho ni un solo movimiento de contacto con este grupo parlamentario

él solo por su mala gestión del diálogo y de la pluralidad de este parlamento y de euskadi

es llamativo que el único grupo que no haya presentado una enmienda a la totalidad sea el del partido que utiliza como recurso electoral y sin escrúpulos la seguridad

el partido popular que ha llegado a proponer el delirio

y entendimos que esta era una señal de que se encuentran cómodos con la propuesta unilateral del gobierno

que se han abierto conversaciones entre los tres grupos partido nacionalista vasco partido socialista y partido popular

eta askatasuna murriztu nahi duen horrekin atera nahi duzue lege hau con este panorama complejo desde elkarrekin podemos voy a presentar con el tiempo que me resta

y nuestro trabajo respecto al proyecto de esta ley para empezar este proyecto de quinta modificación y subrayo que es la quinta

nos ha resultado insuficiente para abordar los desafíos actuales en materia de seguridad con esta modificación parcial se da continuidad a un modelo policial restringido

en el que desde elkarrekin podemos entendemos que deben enmarcarse las políticas de la policía vasca ya lo decíamos en la enmienda a la totalidad que hemos registrado

desde múltiples perspectivas que pueden agruparse de acuerdo con el nivel de análisis que adoptan el individuo la comunidad el estado la región el mundo

las guerras los desastres medioambientales los conflictos comunitarios la inseguridad alimentaria las violencias machistas las amenazas a la salud etcétera

que implícita o explícitamente privilegian prevención frente a represión

bi mila hogeita hamar agendarekin la seguridad humana atiende a la violencia estructural

y las injusticias sociales mediante políticas públicas integradas la seguridad humana se define como la condición de vivir

contempla un abanico de amenazas que pueden atentar contra la vida y contra el bienestar de las personas eta guk proposamen bat

desde esta visión la seguridad no es cosa solamente de policías jueces o prisiones sino del conjunto de la ciudadanía y de las instituciones la política de seguridad que proponemos es participada es integrada

egin behar zaio para nuestro grupo parlamentario tanto en el preámbulo exposición de motivos del texto que se nos ha presentado como en el desarrollo y articulado de este proyecto de modificación de ley

a un modelo de institución policial encajado en el marco de una definición muy restringida de seguridad y que no da respuesta a los desafíos que se nos presentan en la actualidad desde esa visión que entendemos que es reducida y cortoplacista

y en los cambios que proponen están ausentes la prevención y la generación de condiciones adecuadas para que la policía pueda afrontar otros desafíos para la seguridad como son aquellos que atentan contra el bien común por ejemplo los delitos medioambientales en su sentido más amplio delitos contra el ordenamiento territorial y urbanismo

también están ausentes los delitos contra los derechos laborales o la formación para protección del derecho de huelga la formación para proteger

también se echa de menos todo lo que tiene que ver con los grandes delitos fiscales que son el expolio del patrimonio de todas

este proyecto de modificación de ley de policía da continuidad a un modelo obsoleto de seguridad y policial

es una modificación poco ambiciosa y pretende cerrar en falso la posibilidad de abrirnos a los grandes debates sobre seguridad que se están produciendo en la actualidad

modifica una serie de fragmentos de una ley que data de mil novecientos noventa y dos casi treinta años de ley y este sería su quinto parche que anda que no ha llovido

ha corrido mucha agua debajo del puente de euskadi más bien unas cuantas riadas

de carácter político económico cultural social

a todo esto además sería necesario agregarle los diferentes cambios que se han realizado en este tiempo en materia legislativa como la propia ley de ordenamiento del sistema de seguridad pública y también son muchos los desarrollos que se han realizado en la materia a nivel internacional es más el paradigma

es posterior a la ley tiene su origen en mil novecientos noventa y cuatro presentando una modificación parcial de la ley y no una revisión completa de la misma se pierde la oportunidad de realizar una revisión profunda del modelo policial a través de un debate más amplio más participado más ambicioso y más estratégico

un debate que por diferentes motivos nos debemos como sociedad

es necesario tener que revisar el modelo de seguridad y policial por ser este último restringido y por estar fuera de las reflexiones de las propuestas y de experiencias más innovadoras y porque se trata del quinto parche que se daría a una ley

encontramos también que en esta ley se quiere desarrollar una idea de una policía vasca homogénea donde se pierden características propias de las policías locales de este modo

las potencialidades y necesidades de las policías locales quedan totalmente diluidas y quedan sin respuesta

menos aun cuando somos firmes defensores de una policía de proximidad y fuertemente integrada en el territorio y en la comunidad en la que desempeña sus tareas una policía que presta servicio en relación directa con la ciudadanía

y en actuaciones de carácter proactivo y no reactivo se trata de construir una política estructurada

debe tener un carácter integral y partir de la base del trabajo de la comunidad considerando la participación activa de los vecinos sin la cual este modelo no funciona es en suma un nuevo estilo de hacer policía

en la actividad cotidiana de los cuerpos de seguridad y sobre todo de la policía local

que abarcan además de las directamente vinculadas con el crimen y con los delitos otra extensa serie de acciones no directamente identificadas

a la criminalidad como son campañas informativas o preventivas diálogo con la ciudadanía actividades administrativas charlas en colegios contacto diario con la ciudadanía

la reducción de las tasas de criminalidad a través de la prevención nos encontramos en la actualidad con un modelo en el que juega un papel singular pero en el que resulta indispensable un adecuado encaje normativo de las policías locales que confirme su situación real

la creación de una ley de coordinación de policías locales un recorrido que ya se viene haciendo en otras comunidades autónomas y que parece según opiniones expertas diversas que es una buena experiencia y que da respuesta a la realidad actual de las policías locales

si analizamos con más detalle tampoco compartimos algunos de los cambios que se pretenden implantar con esta propuesta elkarrekin podemosek sendo defendatzen ditu

eta polizien jardunbidea zuzenbidezkoa dela bermatzeko además consideramos que este tipo de órganos de control

para los mecanismos de control de la actividad de los poderes públicos a la hora de definir su composición y funciones para un correcto funcionamiento de un órgano de control de esta naturaleza es necesario establecer las condiciones para que la oficina

y sea independiente de los poderes públicos a los que tiene que controlar y en el proyecto presentado se propone la creación de un órgano de control y transparencia

y especialistas nombrados por el propio gobierno para elkarrekin podemos esta propuesta incumple los requisitos básicos para la constitución de un órgano de este tipo

especialmente cuando se trata de investigar fallos dentro del sistema policial

que es el ararteko una institución policial eficiente también se conforma dando lugar a agentes de supervisiones como es el ararteko

más aún cuando estamos hablando de transferencia para la gestión de prisiones pero no aprobamos la comisión que propone

para que se fortalezca el trabajo acumulado y la experiencia que ya viene desarrollando el ararteko

y tras un debate amplio participado que incorpore las opiniones y voces de agentes diversos del mecanismo que acabo de citar

la discreta pero estratégica propuesta para reducir a la mínima expresión la articulación de una policía judicial auténtica dependiente de jueces tribunales y fiscalía que desde el ámbito político y los sucesivos gobiernos nunca

y elkarrekin podemos siempre ha reivindicado la existencia de una policía judicial auténtica que depende funcional y orgánicamente de fiscalía jueces y tribunales quedando solo la relación administrativa con seguridad

y con dotación de medios suficientes para el desarrollo de su labor policial independiente del gobierno también es necesario mencionar que la propuesta del gobierno no resuelve las situaciones de inseguridad jurídica que sufren los agentes en relación a sus derechos laborales

a pesar de existir ciertas progresiones en las modificaciones planteadas

que es necesario dar pasos más ambiciosos la policía del país vasco debe ser reflejo de la sociedad vasca en este tiempo deben adoptarse medidas para avanzar

que sean reflejo de una sociedad vasca diversa abierta y plural planteatzen dugun bezala poliziaren ikuspegian giza

para la igualdad estables con recursos económicos personal especializado propio con dependencia orgánica del más alto nivel que permitan diseñar evaluar y orientar las políticas de igualdad e incorporar la perspectiva de género

internas y externas también es necesario avanzar en un modelo y en medidas que permitan el acceso y la carrera

eliminar la distribución de tareas por sexos los suelos pegajosos y los techos de cristal acabar con la brecha salarial implantar medidas para los cuidados y la corresponsabilidad implementar medidas de acción positiva cuando corresponda y adoptar medidas para asegurar una institución libre de discriminación directa o indirecta y de violencias machistas en particular de acoso sexista y de acoso sexual

aurkeztu dugu como decía viendo que el camino que toma la propuesta de modificación

esta enmienda a la totalidad zinez uste dugu lege osoa moldatu

parte hartzaileetara irekita como decía creo que realmente es necesaria una modificación completa de la ley de policía de mil novecientos noventa y dos

a un nuevo modelo de seguridad y a un nuevo de policía previamente habiendo tenido el debate necesario abierto y con la participación de todos los agentes necesarios eskerrik asko

presidenta señorías haré una intervención con dos partes

a favor de la tramitación de esta ley de policía y una segunda parte refiriéndome ya en concreto

elkarrekin podemos obviamente

primera parte tendrá un reflejo no solamente para esta enmienda de totalidad sino también para la siguiente aunque cuando veamos la siguiente del grupo bildu pues también habrá algún planteamiento concreto a lo que ellos

la seguridad ciudadana la objetiva y la subjetiva la del riesgo real y la del riesgo percibido es una de las preocupaciones y ocupaciones en cualquier sociedad democrática la seguridad ciudadana forma parte de los servicios públicos que la política gestiona y administra a la ciudadanía y sin duda conforma un aspecto más

establece con claridad y con mucha sabiduría que esta política este servicio público de seguridad ciudadana corresponde a las instituciones del país vasco

el parlamento quienes tenemos la facultad para legislar sobre esta competencia y efectivamente es lo que estamos haciendo y efectivamente disponemos

que hay que resaltar también para poder tramitar esta ley de una extraordinaria y envidiable capacidad de autogobierno que conviene también cuidar y prestigiar

siempre y especialmente en este tiempo de turbulencias políticas en el que los ataques políticos de ruptura del modelo por un extremo y por el otro amenazan con perturbar la convivencia política y social con grave perjuicio para el interés general de la ciudadanía

los socialistas estamos en el cuidado prestigio y mejora del autogobierno del modelo autonómico

activa y decididamente en la modernización y mejora del autogobierno que hoy y a esta hora pasa por la reforma de la ley de policía la reforma de la ley de policía que se propone contiene una filosofía actualizada medidas de mejora y también más recursos para su materialización

política se plasma en el proyecto presentado se extiende también por las enmiendas parciales presentadas por los grupos nacionalistas vascos y socialistas vascos

de acordar con propuestas de otros grupos parlamentarios es por tanto un proyecto que tiene actualidad y futuro que sirve para hoy y para mañana que quiere atender a la ciudadanía

que atiende medidas socio laborales reclamadas por distintos colectivos sindicales que atiende propuestas de coordinación y mayor eficacia de la policía vasca realizada por los ayuntamientos que es más exigente con las actuaciones policiales porque establece más controles

señorías el parlamento vasco lleva años tratando la necesidad de actualizar y modernizar la ley de policía

por sus interpretaciones respecto a la seguridad que van cambiando por la evolución de los acontecimientos por la remisión de un tipo de delitos por la transformación de otros

una necesidad que además aporta otras políticas de protección de coordinación policial de buenas prácticas de rendición de cuentas ante la ciudadanía y ante sus instituciones señorías los socialistas cuando afirmamos hoy que la policía del país vasco

de los derechos humanos lo hacemos sabiendo que euskadi ya no es un espacio de vulneración permanente de esos derechos no es un asentamiento de terroristas autóctonos de asesinos de extorsionadores y de cómplices de una de las bandas más sanguinaria de la europa contemporánea

todavía queda muy reciente el momento en el que la democracia consiguió definitivamente derrotar a eta que la declaración de derechos humanos de mil novecientos cuarenta y ocho no haya estado operativa en el país vasco hasta finales de dos mil once

como la que se aborda hoy porque hoy se puede hablar con claridad de un tiempo nuevo

y en el que la seguridad tiene una perspectiva más social porque el derecho

han conquistado el espacio que les corresponde conquista de la que los socialistas nos sentimos muy orgullosos

lucha y resistencia frente la barbarie y al fanatismo al que tuvimos que enfrentarnos

en algunos indeseados protagonistas aprovecho este momento para saludar a representantes de sindicatos de policía que nos acompañan que son bienvenidos

al igual que no nos provoca y nos agrada la presencia de cualquier ciudadano o ciudadana que nos visite porque esta es su casa esta es la casa de toda la ciudadanía vasca sin excepción un saludo que hago extensivo a todos los policías

su trabajo y entrega a la seguridad ciudadana y les animamos a proseguir porque les necesitamos porque esta ley para que sea una buena ley necesita

y ustedes lo son señorías iniciar la reforma y mejora de una ley con una apelación al código europeo de ética de la policía resulta más que adecuado en los tiempos que vivimos una ley que se ha preocupada de incorporar la realidad bilingüe en crecimiento mejorando

en la perspectiva de género acercándose decididamente hacía la demanda de la sociedad oportuna y de mucha actualidad es la mención del proyecto de ley

cuando en estos días y al margen de lo establecido en el estatuto de autonomía hay quienes quieren relegarla a un papel subsidiario respecto a policía nacional y guardia civil

recentralización de vaciado del autogobierno que conservadores y extremistas prometen y que no nos ha pasado desapercibido por mucho que a continuación

recurrido una vez más a san concierto económico el proyecto de ley esta quinta modificación mejora en la dación de cuentas a la ciudadanía respecto de las actuaciones de la policía y también de sus autoridades refuerza los mecanismos de evaluación y mejora del servicio policial mejora sus condiciones laborales sus expectativas profesionales

se da un mayor protagonismo a las instituciones y en concreto a este parlamento

se amplía la participación de expertos en el control de la seguridad para evitar sospechas o tentaciones corporativas se regula el uso de armas y medios técnicos de las policías locales se refuerza la obligatoriedad de planificar prácticas periódicas sobre el manejo de protección personal policial se avanza en la idoneidad e imparcialidad de los tutores y supervisores de los cursos de formación se mejora la movilidad estableciendo porcentajes y concurrencia desde otros cuerpos de policía del país vasco la promoción interna se regula de manera más sencilla y se reducen los tiempos de acceso

en cuanto a los principios de igualdad mérito capacidad y publicidad de las convocatorias se definen las garantías de quienes son cesados

de largos periodos de permanencia en puestos de especialidad se suprime el deber de residencia se mejora los requisitos para acceder a los puestos de investigación criminal y policía judicial se regula la figura del funcionario interino en los ayuntamientos

se avanza en la colaboración entre ayuntamientos limítrofes para necesidades específicas se compromete al gobierno en el desarrollo de los reglamentos en un periodo tasado se regula la atención a la carrera profesional las singularidades de la

y se clarifica la de la función directiva se mejora en la regulación de incompatibilidades se faculta al gobierno

las modificaciones presupuestarias necesarias para la implementación

además de estas propuestas de mejoras hay voluntad política de profundizar y acordar en el resarcimiento en casos de insolvencia en el régimen disciplinario en plazos en grados en proporcionalidad en aspectos de interés para la organización de la representación sindical

en la tramitación de las quejas relativas a los servicios de las policías locales sobre prevención de riesgos laborales sobre segunda actividad también sobre estos aspectos

de las enmiendas parciales señorías el debate lleva años haciéndose

de profesionales de sindicatos y de asociaciones ha contado con aportaciones municipales se ha hecho con comparecencias y reuniones de todo tipo se ha hecho con la colaboración de múltiples expertos es hora de pasar a concretar y decidir porque señorías

no lo sepan o parezcan no saberlo en este parlamento tienen derecho a decidir y la decisión que toca hoy es la de rechazar las enmiendas

a la enmienda de elkarrekin podemos compartimos que la seguridad debe estar relacionada

esta afirmación la compartimos en su integridad lo hacemos por convicciones y porque los socialistas la hemos experimentado durante muchas décadas décadas que para poder ejercer las libertades reconocidas formalmente en las leyes de democracia del estado de derecho

lo conseguimos compartimos que la seguridad humana abarca todas las seguridades que la persona necesita la seguridad ante la amenaza y la seguridad ante la necesidad

y transparencia de los órganos de control que se puede profundizar más que se puede mejorar el papel de la policía judicial que se puede profundizar más compartimos que se puede ser más ambicioso en política de igualdad y mujeres el problema a la vez que compartimos todo esto reside están dispuestos a pactar una ley de seguridad o si una vez más el miedo escénico les puede el problema reside

ustedes quieren disponer se atreven a disponer de la suficiente autonomía política para separarse de la burbuja que habitualmente comparten en aspectos de importancia como son esta ley y frente a esto tenemos que ver los antecedentes e incluso también podríamos ver la propia presentación de enmiendas cómo ha sucedido

asuntos de importancia política les incomoda tanto

lo que hacen es competir con bildu para ver quién antes llega diciendo no quién se anticipa diciendo no cuando se trata de abordar aspectos políticos

lo han hecho muy recientemente lo han vuelto a hacer ahora y probablemente se mantendrán en esa posición en este contexto

podemos compartir reflexiones pero nos tememos que mientras nuestras reflexiones lo que pretenden lo que buscan es acercarse y sumar las suyas lo hacen para obstaculizar

de no querer entrar a debatir algo concreto que es ponerlo en un plano excesivamente general excesivamente ambicioso prácticamente inalcanzable y a partir de ahí ya es absolutamente imposible descender a lo concreto

en los siguientes turnos lo dejaré para entonces por

por las que explicado a favor de la ley y por las que he explicado en relación a lo que
interpretamos entendemos de su posición política votaremos no a su enmienda de totalidad eskerrik asko

porque respondiendo una vez más a esa necesidad suya de su grupo de cambio de paradigma constante y universal nos plantean un novedoso modelo de seguridad humana novedoso concepto que se acuña en el informe del de mil novecientos noventa y cuatro

es decir incluiría como usted adelantaba aspectos tales como el salario básico universal el acceso universal a alimentos básicos la sanidad universal la protección medioambiental la transparencia y la participación política etcétera abarcaría en definitiva la práctica totalidad de las políticas sociales sanitarias

de forma que desbordaría una ley que regula sobre todo y pretende regular sobre todo las singularidades del régimen funcionarial policial

la enmienda como usted decía engloba dentro del concepto de seguridad humana tanto vivir libre de temor como vivir libre de

sobre su significado preciso hay quien critica su vaguedad

de las funciones militares y policiales que espero que no sea su voluntad y así es porque se teme que bajo el paraguas el paquete de la seguridad

hay quien añade además seguro que la señora arana que sonríe lo conoce una crítica feminista a este concepto ustedes

lo que pasa es que se pierden en nominalismos les invito a que piensen en lo sustancial mire estamos de acuerdo con que el modelo policial debe orientarse al logro del bienestar social

compartimos eso la policía debe orientarse en un sentido proactivo enfocado a la prevención y resolución de problemas centrada en responder a las necesidades de la ciudadanía

sanitarios respetando siempre los roles específicos de cada institución por todo ello mejor harían ustedes en dejar a un lado de momento

para leer con un poco más de atención lo que en realidad dicen las normas que ustedes critican y pretenden derogar y se lo recuerdo mire el artículo cuatro de la ley de policía del país vasco

para lo cual se coordinará con aquellas otras que desarrollen las distintas administraciones del país vasco para dar respuesta a la marginación social y atenderá a las demandas de los distintos agentes sociales la ley de ordenación del sistema de seguridad pública expresa

esa visión de la seguridad pública focaliza las políticas públicas a la ciudadanía como sujeto activo destinatario de prestaciones públicas y no como antiguamente exclusivamente hacia la seguridad del estado y el mantenimiento del orden público y el artículo dos punto tres de la ley de esa ley expresamente que las políticas de seguridad pública están orientadas a promover condiciones y remover obstáculos para que las personas puedan disfrutar del pleno ejercicio de sus derechos y libertades

reduciendo en la medida de lo posible los riesgos y peligros intencionados o que pudieran perturbar los derechos y libertades de las personas y la seguridad de las mismas

todo esto dice la ley dice la ley actual hitzez hitz palabra por palabra y deberían leer ustedes con más atención porque

no es tan nuevo como ustedes pretenden lo único que haría falta es que se acercasen ustedes a los temas con menos prejuicios de los que se acercan

no se acierta a comprender que pretendan ustedes devolver el proyecto al inicio porque dicen ustedes que es una ley longeva

no es longeva es verdad data de mil novecientos noventa y dos es cierto pero ha sido modificada y actualizada en cuatro ocasiones por cierto mire doscientos noventa y siete leyes

son anteriores a mil novecientos setenta y ocho el código civil es de mil ochocientos noventa y ocho

y la ley de notariado de mil ochocientos sesenta y dos esta ley se ha actualizado y adaptado a los tiempos en cuatro ocasiones

y ha limpiado y ha puesto otra vez el país en marcha también con esta ley tampoco se puede decir que la modificación se trate de meros parches

porque esta precisamente la quinta modificación es la reforma más sustancial y de más calado que ha tenido la ley desde el año que se aprobó

dicen ustedes en su enmienda aunque hoy en la tribuna no lo ha dicho que sería preciso agregar a la ley los cambios realizados en la ley de ordenación del sistema de seguridad pública de euskadi y admito que no dejan ustedes de sorprenderme en realidad dicha ley

ya modificaba la ley de policía en realidad son leyes complementarias que no precisan de integración alguna porque ambas forman parte del vigente ordenamiento en materia de seguridad pública precisamente la ley del dos mil doce acoge el concepto ampliado de seguridad

y abarca mucho más que lo propio de los servicios policiales mucho más

y termino con tres cuestiones más que utilizan ustedes como tótems y que también ha mencionado aquí en su argumentación para

jueces y tribunales permítame decirle que este brindis al sol que usted hace me parece muy bien y comparto

porque usted sabe que es absolutamente inviable someter a la policía vasca a un régimen de funcionamiento como policía judicial ajeno al marco legal que regula aquella policía

para la próxima legislatura en cortes generales que ahora comienza deberes que todavía no han hecho mire además de esa las doscientos noventa y siete leyes que siguen vigentes desde

que la simple edad o el paso de los años es materia suficiente para arrinconar algo eso pretendían hacer con los partidos políticos cuando ustedes nacieron y parece que vale para todo segundo tótem

se nos reclama que profundicemos y trabajemos todos los aspectos que sean necesarios para avanzar en la igualdad

en el ámbito de la policía vasca en este terreno y nosotros estamos de acuerdo por eso precisamente

que ustedes y nosotros compartimos en el tema de la igualdad entre mujeres y hombres podemos alcanzar acuerdos y avances ahora bien

si se devuelve la ley se perpetúa la situación si se aprueba la ley se puede avanzar así de sencillo

el marco legal y funcional que proponen respecto a las policías locales usted dice que habría que sopesar las diferentes leyes de coordinación de policías locales de otras comunidades autónomas y crear una ley de coordinación de policía local olvida usted que ya tenemos nuestra propia ley de coordinación de policías locales

y le aseguro además que va mucho más lejos que cualquier ley autonómica vigente en esta materia tres tótems que no se sostienen

en vez de reformar la actual como siempre con ese complejo de que las cosas tienen que empezar con ustedes mire suena a pura desgana o quiero creer que no

una actitud obstruccionista permanente en definitiva palabras palabras como diría la gran mina parole parole mire la reforma es positiva las mejoras con posibles

para avanzar pero ustedes en vez de avanzar proponen parar y además lo hacen acusando al gobierno de falta de voluntad de negociación nuevamente parole parole parole

bueno yo me encuentro sorprendido

lo primero la falta de argumentos políticos a la hora de rebatir nuestra propuesta y los que se han dado cogidos con pinzas

y sobre todo porque el argumento central que se ha utilizado para confrontar nuestra postura es

tipo de voluntad de acuerdo a la hora de tratar esta cuestión entonces yo voy hacer dos preguntas una por qué no nos han llamado

por qué solo han hablado con el partido popular de lo que luego hablaré que creo que tiene

y dos parece que tampoco se han comunicado mucho con sus compañeros del partido socialista que estaban muy de acuerdo con cosas que planteábamos pero escuchando al señor prieto y escuchando al señor prieto además criticar la propuesta del partido popular

parece ser que el partido socialista no se ha enterado de que entre ustedes y el partido popular

hay muy buena sintonía de cara aprobar esta ley

tanto acuerdo hay respecto del paradigma si tanto acuerdo hay respecto de la amplitud que tienen que tener las políticas de seguridad a su carácter integrado a la necesidad de coordinación entre

por qué no hemos tenido ni una sola reunión para hablar de la ley de policía y de su futuro respondan porque

ha sido hoy en esta tribuna ha sido hoy en esta tribuna no esperen ustedes

vayamos de buenas a primeras a plantearles un sí cuando ni siquiera nos han preguntado qué es lo que queremos qué es lo que proponemos y qué es lo que pensamos

propio sí planteamos las ideas de elkarrekin podemos en las enmiendas parciales sí claro y en las enmiendas a la totalidad y encima si usted observa

verá que es de coherencia absoluta con lo que llevamos diciendo desde que elkarrekin podemos llegó a este parlamento por lo tanto interés electoralista ninguno es más si por nosotros fuera este debate podría hacerse mejor un mes más tarde que el día de hoy bastante más positivo sería

por lo tanto la única conclusión que yo puedo sacar de la respuesta

es que quienes realmente no se quieren salir de su zona de confort son ustedes se mantienen muy cómodos

junto al partido popular miran a la derecha tienden la mano al partido popular para afrontar una reforma de la ley de policía ni más ni menos

tendéis la mano al partido de la brigada política de la policía patriótica

con un partido que considera que la policía es una herramienta para ganar poder socavar la democracia y socavar el estado de derecho y que además esta públicamente ahora siendo esto probado es el compañero de viaje que ustedes han elegido y es la zona de confort en la que ustedes han elegido estar sin hacer un solo análisis crítico de las políticas de seguridad que deberíamos de tener en este país

si usted critica la poca novedad del concepto de seguridad humana difícilmente puede defender una ley que es más antigua que el concepto de seguridad humana y que evidentemente no se corresponde con los tiempos que nos tocan vivir con los retos que nos tocan vivir y esto no solo lo digo yo sino que lo dice la propia consejera cada vez que nos trae los análisis sobre

y que desde luego no se corresponde con toda la serie de cuestiones que han sucedido en este país en los últimos años porque todos sabemos que necesitamos una actualización del modelo policial en euskadi porque vivimos en muchas materias un nuevo tiempo en euskadi

con nadie más así que han elegido conscientemente de forma unilateral caminar de la mano con quienes tienen la visión

más punitiva y más arbitraria de la institución policial por lo tanto nosotros y nosotras estamos realmente preocupados del camino que puede tomar la policía vasca la ertzaintza y la policía local

de la ley además voy a resaltar

y defensa ciudadanía estado y que eso se introduce en la ley de ordenamiento del sistema de seguridad vasco

uno de los temas que se trata a la hora discutir sobre este paradigma y que precisamente resalta el partido popular en sus enmiendas que tiene que ver directamente

se regule el uso de las armas por parte de la policía local bueno a propuesta del partido

se aumenta el uso de las armas por parte de la policía vasca y concretamente de las policías locales han elegido un compañero de viaje que nos quiere además

que es falsa que no existe porque no hay un problema que resolver sobre si armas sí o armas no el problema que hay que resolver es cuál es el modelo de seguridad que tenemos qué tipo de policías queremos en nuestras calles y cómo se invisten de autoridad y confianza a la institución policial

de policía esto es si la autoridad obtenida por los agentes es debido a su monopolio utilización de la violencia

la cercanía a la ciudadanía y la capacidad de solución de conflictos y a mí me gustaría que a los agentes se les respetará principalmente por su buena labor y por su ayuda y no por el hecho de portar un arma y eso tampoco se quiere debatir

porque si debatimos sobre esto habría que cuestionarse muchas cuestiones sobre la cultura y organización policial que no se quieren poner a debate

otra vez ante esta dicotomía esto es a quién defiende la policía y quién protege a la ciudadanía

y por mucho que esté descrito en la ley

que la policía debe proteger a la ciudadanía si ustedes tienden en la dirección que plantea el partido popular están diseñando un modelo de policía que protege al estado y no a la ciudadanía porque no hay más que ver

patriótica nosotros lo tenemos claro la policía protege a la ciudadanía protege sus derechos y protege sus libertades y aquí está claro en qué espejo queremos mirarnos si queremos mirarnos en el espejo

con abusos policiales constantes y altísimos índices de criminalidad o en el de países con altos

y mirar a la derecha mirar al partido popular es elegir el primer espejo y esto es muy grave para terminar

al quinto parche de una ley obsoleta no va a dar pase a una reforma que entendemos que es miope y que es cortoplacista de una ley de mil novecientos noventa y dos

y policial anticuado y que genera problemas constantes a los propios policías y a la ciudadanía este modelo no responde a los desafíos del siglo veintiuno no vamos a dar paso a un proyecto de ley que lleva diez años en un cajón que se ha traído sin debate abierto

porque ustedes en ningún momento se han puesto en contacto con nosotros pero elkarrekin podemos tiene mucho para decir y mucho para aportar en esta cuestión tiene una propuesta con medidas concretas y con medidas tangibles hemos sido el grupo parlamentario que más

y una institución policial de proximidad para nuestro tiempo para los barrios pueblos y ciudades de hoy y de mañana que se desarrolla

en el marco del paradigma de la seguridad humana de los estudios críticos de las perspectivas ecologistas y feministas y que está abierta a la influencia

y países con altos estándares en el respeto a los derechos humanos y muy bajos índices de criminalidad que promueve la igualdad la emancipación social ético político en la práctica que pone en el centro a las personas

si el portavoz de un grupo político importante como el suyo se presenta aquí ante una ley sectorial es evidente que está en una disposición política que no tiene absolutamente nada que ver con el contenido de esa ley y las posibilidades de modificación de esa ley

es evidente que usted está en la totalidad de la política es evidente que usted está

que lleva desde hace meses tratando de demostrar que este gobierno está aislado este gobierno está en minoría este gobierno no tiene capacidad de

lo han hecho en más ocasiones lo han hecho en los presupuestos lo hacen aquí y lo hacen siempre que llega algo importante porque en el fondo ustedes tienen todavía no resuelto de inmadurez política a la hora de ser capaces de llegar a acuerdos en asuntos importantes para la ciudadanía que exceden de lo que es su preocupación o de lo que es su interés partidario obviamente aquí no hay ningún grupo absolutamente ninguno por la fuerza que ocupa por la fuerza que tiene en la sociedad que esté en condiciones de imponer su modelo ideológico al cien por ciento al conjunto de la sociedad y por eso hay que pactar y cada vez que sale aquí en los últimos meses lo trata de hacer con un discurso aparentemente muy ideologizado para poner inalcanzable la posibilidad de acuerdo y por eso

que decir un no a una cosa decir no a la otra y decir no a la siguiente

es plantear un gasto imposible la forma de cargarse una ley de policía es plantear un modelo imposible la forma de cargarse una ley de policía es plantear que poco más o menos tiene que dar respuesta a la seguridad

ahora qué vamos a discutir la carrera profesional qué vamos a discutir los problemas limítrofes entre los ayuntamientos en la seguridad eso es en fin eso es el chocolate del loro y obviamente

porque está en lo global y entonces qué es lo que hace

fíjese no es tiempo no es tiempo porque son elecciones oiga

han sido las sucesivas prórrogas de trámite parlamentario que hemos pedido los grupos voluntariamente

y por lo tanto este es el momento que toca a una ley que se ha presentado ya hace muchísimos meses casi un año bueno así están las cosas

la seguridad ciudadana depende de que haya convocatorias electorales o depende de que tengamos un compromiso político de todos los grupos en nuestras facultades de legislar sacarlo adelante a qué viene esa excusa a qué viene ese lloriqueo dice

para esconderse para ponerse como cortina para ponerse detrás de él para no ser capaz de luego resolver y concretar nada dice no me han llamado

es que las tecnologías permiten ida y vuelta en las llamadas

si tiene voluntad llame pero usted no tiene voluntad y por eso presenta una enmienda de totalidad

una ley de plano no venga luego lloriqueando que es que lo que quiere es pactar esto lo otro y que se puede aquí y se puede allá y luego ya

es que he hecho una crítica y que no me he enterado porque parece ser que tenemos que llevar al partido popular cargadores oiga mire con el partido popular

porque sí tenemos esa autonomía política no nos vigila nadie no estamos pendientes de competir con nadie

sino que podemos expresar con claridad aquello que pensamos y efectivamente

algún pronunciamiento político muy grave que está haciendo el partido popular el conjunto del estado y que no ha sido matizado en el país vasco y qué y qué pasa

del pluralismo político y qué concepto tiene usted de poder debatir y de poder expresar ideas es que en fin es un planteamiento absurdo le digo oiga

profundizar en los sistemas de control en los sistemas de transparencia en la política de igualdad oiga que no se han enterado que la critica oiga le digo que se puede mejorar ahí claro

esta ley es la mejor del mundo no tiene más margen político no puede ir más allá claro que tiene más margen político y que puede ir más allá y eso depende de la voluntad del conjunto de esta cámara

oiga si usted quiere sumar no tenga ninguna duda de que aporta un trozo no tenga ninguna duda de que se lleva un espacio no tenga ninguna duda de que puede acercar a sus posiciones políticas

presidente andrea señor martínez quiero confesarle que es usted enternecedor

por la carga cínica que llevaba detrás que luego

de traerme a la realidad y sacarme de esta tranquilidad en la que

el tema en periodo electoral ya le ha contestado el señor prieto y no voy a entrar en cuál es el procedimiento

en todo caso quien ha traído usted aquí la campaña electoral quien ha traído usted aquí el debate electoral quien ha estado usted hablando con el señor casado

iglesias o qué ha sido usted los demás estábamos hablando

el debate para hacer un mitin y es legítimo pero no nos acuse a los demás de traer esto en campaña electoral mire usted con esa manera tan de hablar nos ha preguntado por qué no le hemos llamado

a negociar una ley a quien está pidiendo que la ley se devuelva

usted pero es que le voy a decir más no no antes antes cuándo a principios de legislatura el año pasado cuándo ustedes todavía no existían y estaban pensando en venir a las instituciones oiga mire vamos a ser serios ya se lo ha dicho

el señor prieto vamos a ser serios mire no les hemos llamado porque ustedes han pedido que la ley se devuelva

algo testimonial me limito por mantener ese gran paradigma de la nueva seguridad y decir que esto hay que empezarlo de cero como todo con ustedes todo hay que empezarlo de cero no no es que ustedes no se han limitado a algo testimonial a presentar una enmienda de totalidad

maniobrado para que el proyecto de devuelva no se han limitado a presentar

una enmienda de totalidad y además con el mismo partido popular de la policía política

señor usted y ustedes que luego iremos con ellos

con el mismo partido popular que no sirve para aprobar la ley parece ser porque están contaminados sí sirve para devolver el proyecto o sirve para reprobar al consejero darpón presentar propuestas de modificación de la normativa en relación con el comercio mire yo lo que les pido es que sean sinceros y que no sean

como interlocutor para hacer política por todas esas cosas que usted ha señalado es su decisión nosotros hemos dicho

vamos a poner vetos a nadie no vamos a poner vetos a nadie por lo tanto si usted cree que están inhabilitados dígalo pero luego no maniobre por detrás con ellos para

mire ustedes con la devolución ayudan a dificultar todo aquello que dicen defender ustedes dicen defender

que se rompan los techos de cristal y ustedes con la devolución hacen justo lo contrario hoy mismo hemos tenido el conocimiento de que

porque no hay reserva legal y ustedes si su estrategia

salga adelante y se devuelva sigue adelante seguirían manteniendo esta situación en vez de romperla porque ustedes se pierden en palabras se lo he dicho se pierden en grandes enunciados se pierden en filosofías

hacen mutis por el foro y mientras siga así va a ser difícil les podemos llamar todas las veces que haga falta pero hace falta que cuando se les llame haya alguien con capacidad

con esta reforma legal se va a resolver el debate sobre el modelo policial en este país

o dicho de otra manera solo hay una manera de organizar el servicio de seguridad en este país hay alternativas

pensar alternativas la actual es la única visión posible sobre cómo organizar la policía vasca la única manera de dotarla de recursos

nos servirá para los siguientes treinta ahora con ciertos retoques cosméticos cuando se nos trajo este proyecto de reforma hace tres años manifestamos entonces ya que solo se tocarían algunas cuestiones superficiales

hoy constatamos eso no se ha querido abrir el melón no se ha querido enfrentar el debate no se ha querido tocar el modelo no se quiere hacer un debate

político y según veo por las noticias que ayer salieron basta un debate salarial con la incorporación de algún complemento económico para dar pase a esta ley propuesta que por cierto viene de la mano precisamente de un partido que sí que ha hecho una propuesta de fondo y que sí que ha querido romper el tablero subordinando a la ertzaintza a la prevalencia de las fuerzas y cuerpos

efectivamente les preguntamos cuál iba a ser su actitud frente a la enmienda a la totalidad

cuál iba a ser la sintonía que con ustedes parece están empezando a desarrollar esta ley niega la posibilidad de este debate

exposición de motivos nos explicita que esta reforma no va a tocar el modelo es curioso porque es un párrafo escrito en letra cursiva

respecto al resto de las cuestiones meramente técnicas que hay en la exposición de motivos porque sí que tiene calado político y parece que ha sido

el modelo policial que propugnaba la ley de policía del país vasco es una realidad asentada y reconocida socialmente se ha acabado el debate no hay posible reflexión

no hay alternativa o este modelo o la nada agerraldietan entzun dugu eskaera zabal bat

echamos en falta en este proyecto de ley una mención más concreta e inequívoca respecto al modelo de policía que debe regir

ahora de la mano del pp también nos mencionaba la necesidad de repensar en el modelo

se clarificase el modelo policial que se desea implantar una vez comprobado que la actual reflejado en la vigente ley de policía

ahora parece que abandonan esa posición esa oportunidad de bajar al fondo y de hablar del modelo por priorizar algunas mejoras corporativas tal vez las propuestas de unos y de otros no sean compatibles sean contrapuestas

pero sí que al menos nos solicitan un debate abierto amplio

todas las posibilidades pero no solamente el punto de vista de algunos grupos de oposición los sindicatos más o menos críticos con el departamento y con al ertzaintza

los principios de la ertzaintza abril del dos mil trece el mundo

apuesta por un modelo para que la ertzaintza recupere

qué sucedía en dos mil trece se ha producido ese proceso se ha traído ese cambio de modelo de tal manera que

para consolidar el modelo policial luego no estaba consolidado en el dos mil dieciséis no es lo que pone en la exposición de motivos

se ha buscado ese acuerdo con nosotros no se ha hablado lo único que se ha hecho es traer una ley

merezi dutenak dos recursos es decir plantilla y presupuesto ante una evolución favorable con menor criminalidad

hay que incidir en las mismas prioridades que había hace treinta y cinco años por estar en esos parámetros del pasado

adecuadamente a las nuevas realidades a los nuevos retos a las nuevas preocupaciones de seguridad que tiene este pueblo ante esta nueva realidad por qué emplear idénticos recursos en seguridad por qué no se reorganizan de otra manera por qué se mantiene el mismo ratio de policías por habitantes por qué tiene que haber ocho mil ertzainas

a todo esto el presupuesto en dos mil doce para la ertzaintza era de seiscientos cincuenta y ocho millónes

una caída en la recaudación en el año dos mil trece pasando a quinientos ochenta y dos es decir setenta y seis millónes menos entonces la consejera beltrán de heredia

un servicio de calidad terminado el ejercicio dijo que se habían cumplido los objetivos y que se había conseguido la eficiencia hoy en día volvemos otra vez a los

dos mil doce es decir se puede prestar este servicio con setenta y seis millónes más

recursos finitos para necesidades infinitas se emplean bien estos recursos ayer el pp nos vendió la carrera profesional

como la piedra de toque para aprobar esta ley hemos considerado esta como algo cosmético como maquillaje pero es que es peor aún porque ahora parece que la simple cobertura para una mejora salarial para dar cauce a una reivindicación corporativa sería suficiente para aprobar esta ley más dinero en sueldos para una plantilla que también va creciendo

es sostenible este planteamiento algunos sindicatos han sacado ya las tablas con los nuevos complementos no por competencias profesionales además sino por mera

y parece que ya se empiezan a frotar las manos es posible semejante esfuerzo presupuestario hay alguna memoria económica que lo esté avalando por qué estas prebendas para un sector de funcionarios públicos cuando el resto está afrontando recortes

interinidad cuando la carrera profesional de osakidetza está congelada por qué

y les querría preguntar a ver si esto es así si lo que ayer salió todas estas informaciones son ciertas señores del pnv y del psoe ya que la señora beltrán de heredia no puede responderme es real este

tercer punto cuál es la distribución funcional actual se habla mucho de la palabra integral les tengo que decir que en el estatuto no aparece

interpretativo cómo lo interpretamos cómo se interpreta el término policía integral

puede y debe de hacer absolutamente todo es la ertzaintza policía integral o es la policía vasca es decir ertzaintza más udaltzaingoa

las que completan un servicio integral de seguridad para este país porque es muy distinto

policía municipal que es la verdadera policía de proximidad desde nuestro punto de vista no se está dando una duplicidad

de protección civil de bomberos o cruz roja es una buena forma de organización es un buen reparto funcional de cada uno qué es lo que debe de hacer dónde se establece quién debe asumir cada función es por la fuerza de los hechos es por el que más rápido lo asuma es por el que primero llegue

en esta ley se debería de tomar en consideración pero este debate nuevamente se obvia udaltzaingoak eta ertzaintzak izaera oso ezberdina dute hori ez bada

ezegoki eta kasu batzuetan garatu gabe ere agertzen direnean efectivamente porque tenemos otro problema que no se va a resolver con la presente

de la ley de mil novecientos noventa y dos que es que precisamente tenemos un corpus legal disperso y caótico que se va a evitar racionalizar y cohorentizar en un debate global el primer párrafo del proyecto de ley que ahora se nos está presentando nos confirma que la ley quince barra dos mil doce de ordenación del sistema de seguridad pública de euskadi desgajo desgajo de tal regulación los aspectos comunes al conjunto de la seguridad pública tales como la academia vasca de policía y emergencias la coordinación

o los mecanismos de coordinación cooperación policial efectivamente en vez de tener un solo corpus jurídico legal en una sola ley completa

se desgaja en diferentes leyes que hay que interpretar sometidas además a la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado por no hablar de otros decretos

cooperación pero yo me pregunto cómo si esta ley quince barra dos mil doce no se toca y la cuestión es que en vez de dar esta respuesta legislativa coherente de conjunto unificada

ciertos parches se reformará por medio de esta reforma la academia vasca regulada en aquella ley quince barra dos mil doce porque parece que hay una emergencia

único órgano en los procesos de selección lo cual nos genera además un problema un problema práctico este sistema está relegando la función que tienen los ayuntamientos

comprobando arkaute está boicoteando y está obstaculizando

que se resisten a ese modelo de convocatoria unificada una convocatoria unificada que lejos de cambiar en los parámetros ahora nos anuncia la señora consejera

convocatoria nos oponemos a este sistema nos oponemos frontalmente a este sistema la coordinación con policías locales no es correcta porque todavía se realiza desde una mentalidad de jerarquía o sometimiento de la policía local de udaltzaingoa con respecto a la ertzaintza

porque todavía están sin implementar las previsiones del artículo dieciséis punto seis del estatuto para revertir la intervención que en las últimas décadas

en el mantenimiento del orden público en la comunidad autónoma parches parches y más parches en vez

globalizadora y de afrontar el todo euskal poliziak kontuak eman behar dizkio

de policía escocés que nos explicó el modelo de policía que se había implantado en su país un modelo que él mismo había ayudado a construir

una policía que busca continuamente su legitimación ante su sociedad por medio de la transparencia por medio de la dación de cuentas y por medio de la asunción de responsabilidades una policía que apenas porta armas algo que facilita la comunicación la confianza y la empatía con su ciudadanía

que son quienes deben de intervenir en aquellos operativos que precisan del empleo de armas de fuego en escocia ratio policial por habitante cercano a la mitad del ratio policial que tenemos en este país y con el doble de participación de la mujer de la que tenemos

que solo emplea la fuerza como último ratio cuando la comunicación la persuasión

y esto es lo que queríamos un modelo que existe un modelo que funciona un modelo que es posible un modelo que está aquí cerca ziur nago

presidenta señorías en esta intervención seré más breve porque parte de los argumentos del debate estaban referenciados a que salga adelante la tramitación de esta ley y

y específicamente en esta intervención hablaré de la enmienda de totalidad de bildu

es una enmienda a mi juicio cargada de insinuaciones de amagos de quiebros que no terminan definiendo nada y que esconden lo que creo que son los dos principales motivos para oponerse a esta ley se explicite o no

o se utilice otro que es la animadversión

y su empeño en querer desnaturalizar la necesidad y funciones de la policía vasca para justificar lo injustificable es recurrente cuestionar el modelo policial hablar del nuevo tiempo retrotraerse a la legislatura anterior

en cuenta a nadie para este proyecto o criticar la coordinación y distribución de funciones

y las policías municipales y la autonomía municipal como tampoco podía ser de otra forma y aprovechando el momento se

el que se vayan de la guardia civil y de la policía nacional y reprochan que el proyecto no trate el repliegue

lo real el proyecto de ley que nos ocupa lleva muchos meses de tramitación y el tiempo transcurrido como se puede apreciar en esta sesión

las comparecencias del gobierno sindicatos asociaciones y expertos han ido dejando ideas y propuestas que han sido recogidas por el gobierno

por otros grupos el tiempo transcurrido y el trabajo realizado ha servido para que las enmiendas de totalidad hoy pudieran estar en minoría

ha servido para que parte de los protagonistas que han hecho estas aportaciones y que algunos nos acompañan como es obvio me refiero a la parte sindical hayan expresado el reconocimiento y la gratitud por las cosas que hemos decidido incorporar

en este trámite legislativo contrariamente a lo que dice bildu la voluntad de acuerdo y de máximo consenso está vigente en los autores de la iniciativa

sino porque es una necesidad no hace falta ser matemático para saber que el gobierno necesita apoyos más allá de los que tiene de los grupos del gobierno

que sin acuerdos de terceros no es posible sacar adelante otra cosa distinta

en él ciertamente la distancia entre bildu y el proyecto es enorme y la enmienda de totalidad aunque no lo expresa con claridad esta referencia en otras intervenciones que hemos tenido en esta cámara

en la que se ha cuestionado permanentemente el número de efectivos también se ha hecho hoy en más de un veinticinco por ciento

paralizar las ofertas públicas de empleo y también se ha cuestionado sistemáticamente las intervenciones policiales en una serie de episodios que todo el mundo recordará bildu ha negado la necesidad de ocho mil agentes

de la falta de médicos de enfermeras de profesoras de técnicas de empleo es decir que si no hay más de todo esto es porque hay demasiado policía y por lo tanto el policía de alguna forma

de esa escasez de medios según ellos en otros servicios públicos

de seguridad en cierto modo desde su filosofía desde la filosofía de bildu sobran muchos efectivos porque

sí que sea una policía de entretenimiento más o menos es decir de charleta y que para evitar otros problemas

se abstenga de intervenir efectivamente para no intervenir para ir de charla y para

no el veinticinco por ciento sino el noventa y nueve por ciento señorías

han sido reiterados y las acusaciones de desproporcionalidad ante hechos violentos y de riesgo también

la enmienda de bildu de rechazo a la ley no se sustenta ni en el modelo

de delitos actuales ni en el protocolo para el uso de las armas ni en la autonomía municipal

ha perseguido a terroristas de eta a delincuentes que para ustedes son héroes a asesinos que para ustedes son activistas políticos en defensa de la libertad de su patria inventada a quienes durante décadas asesinaron

y crearon decenas de miles de víctimas por el hecho de tener una actividad profesional o una afiliación política

nacismo y genocidio y ahí sí que hubo persecución y exterminio

de expresión con todos estos antecedentes con todo lo que han trabajado y trabajan para tapar lo que pasó

para hacer pasar por buenos a los malos por negar la condena de tantas atrocidades que se han cometido cómo se atreven hablar de modelos de seguridad de seguridad ciudadana

auto inhabilitados para proponer modelos policiales y para ser creíbles en sus planteamientos de aparente preocupación por la seguridad ciudadana cuando todavía tienen grandísimas deudas pendientes con la calidad democrática de la defensa de los derechos humanos en este estado de cosas

existentzia baizik no hace falta usar palabras

su problema es la existencia misma de la policía en concreto de la ertzaintza lo fue en mil novecientos noventa y dos

va en la parte de atrás de los coches para ustedes el problema es la ertzaintza y por ello ustedes tienen un problema o mejor dicho dos mire yo le reconozco que su postura es respetable

no se oculten tras extraños circunloquios complejas alusiones al contexto sociopolítico hablen claro porque lo hemos debatido muchas veces en este parlamento y en la calle

dicen ustedes en su enmienda que hay defectos estructurales que el proyecto de ley no aborda dicen ustedes que se crean cuestiones cosméticas pretenden una vez más que el proyecto de ley es autocomplaciente bien para ustedes todo es autocomplaciente

es autocomplaciente cualquier iniciativa del gobierno vasco es autocomplaciente el lehendakari es autocomplaciente

es eh bildu repartiendo autocomplacencias a todos y para todo y sin asumir nunca la responsabilidad de una decisión la exposición de motivos de la ley no es autocomplaciente es justamente lo contrario detalla compromisos

probablemente no les guste y es su derecho pero lo hace

con una sociedad abierta plural bilingüe y constituida por hombres y mujeres iguales en derechos

es mejorar el compromiso de la policía vasca no hay autocomplacencia cuando se pretende mejorar y hacerlo con una reforma de calado en muchos aspectos eso sí lo admito

aborda fundamentalmente aspectos relacionados con el régimen jurídico aplicable a los funcionarios y funcionarias de la policía del país vasco aborda los aspectos relativos a esta ley no aborda otras cuestiones que implicarían cambios en otras leyes distintas estas cuestiones ajenas a esta ley

para no hablar de esta ley sigamos con el catálogo de circunloquios hablan ustedes de una supuesta dispersión normativa

sé que las normas se interrelacionan entre sí conformando un ordenamiento coherente sin necesidad

la relación entre leyes decretos y órdenes se funda en el principio de jerarquía no existe ningún caos normativo porque exista una pluralidad de normas subordinadas unas a otras es lo lógico y lo normal su explicación de la dispersión normativa en el ámbito de la seguridad pública es un homenaje al circunloquio lo que tengan que cambiar en la ley quince barra dos mil doce de seguridad ciudadana se abordará en su momento en cualquier caso dicha ley

al conjunto del ordenamiento vasco en materia de seguridad pública este concepto no solo engloba lo puramente policial sino que abarca cuestiones como la gestión de emergencias

se trata ahora lo que se plantea es poner al día el marco jurídico regulador de las personas profesionales de la policía vasca un marco estancado en su revisión desde hace ya más de ocho años y que viene demandándose por la generalidad de los agentes

nos hablan de una supuesta subordinación a la ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad

resulta que no es de aplicación a la policía vasca solo son de aplicación los artículos

porque la regulación se encuentra en otra ley orgánica en el estatuto de autonomía

ninguna otra ley orgánica que no sea una reforma estatutaria es muy claro el legislador por mucho que algunos lo anuncien en campaña electoral dentro de sus estrategias electorales

la prevalencia de las fuerzas estatales sobre la policía vasca pero tampoco el parlamento vasco puede legislar sobre las funciones o limitaciones de funciones de las fuerzas y cuerpos policiales estatales

no tiene fundamento porque es la junta de seguridad el foro que acoge el trabajo en relación con estos temas

y esto ustedes lo saben porque han sido ustedes eh bildu

algo parecido en la ley de policía que han promovido impulsado y aprobado en navarra

algo similar de lo que aquí no rechazan anatemizan es

y no le den más vueltas no hay subordinación no mareen más no nos mareen con sus obsesiones sin base

a ustedes no les gusta la ertzaintza está claro yo no le voy a dar más vueltas

las personas que conforman el servicio público de policía piensen en lo que supone volver a estancar el proceso de reconocimiento de su carrera profesional o dejar en la cuneta actualizaciones laborales como los riesgos profesionales y el régimen disciplinario y por cierto no es verdad que se esté priorizando la carrera profesional

en marcha desde hace años desde el año dos mil once y precisamente el martes pasado si no estoy equivocado se aprobó la reanudación

piensen lo que supone volver a postergar una legislatura más la aprobación de la puesta al día que se viene posponiendo ya demasiado tiempo mire preguntaba usted si es real

la simple información sobre una supuesta negociación o acuerdo entre el partido popular el partido socialista y nosotros sobre esta ley mire lo que le digo es que lo que es real

de sacar adelante la ley lo que es real es nuestra voluntad de mejorar el servicio público de la policía que incluye en este caso la carrera profesional y que se haga

están ustedes tan empeñados desde el primer momento hasta el último en devolver el proyecto al gobierno lo han dicho claramente y han atendido a sus razones

ustedes han citado a comparecientes

pues bien ninguno de ellos ninguno de ellos respondió afirmativamente a la pregunta de si era necesario devolver el proyecto y comenzar por uno nuevo

ignoran ustedes todo un proceso de reforma legal que permite responder eficazmente a las demandas de las personas y colectivos que han comparecido en el parlamento la mayoría de ellas han demandado una nueva ley

de que esta vez era la buena y nosotros estamos convencidos y comprometidos en que esta va a ser la buena a la tercera va a ir la vencida lo vamos a hacer a tiempo para que aspectos largamente demandados por los ertzainas se puedan poner en marcha sin más dilación

estamos abiertos a mejorarla y estamos abiertos a hablarlo con todos pero no hagan plantas o sea no se les oculta a ustedes que presentar una enmienda a la totalidad con petición de devolución del proyecto no es la mejor manera de posicionarse para negociar y claro

no pretenderían ustedes que los socios de gobierno que el gobierno se quedase mirando como ustedes devolvían el proyecto de ley mire ustedes podían haber optado por otra vía por una vía más abierta al debate por una vía más pragmática pero han preferido la de siempre eh bildu está ahí la oposición frontal

es que ustedes en esto también siguen presos de su historia y que su historia aún

voy a empezar respondiendo al señor prieto que en el anterior turno

hare primero una mención a lo que diga elkarrekin podemos y después

pero parece que no se ha visto usted satisfecho por lo que yo he planteado porque usted ha tenido que esgrimir insinuaciones amagos

sino la valoración de intenciones que usted tal vez traía preparada o venia predestinado a escuchar y para poder concluir al final que yo tengo una animadversión

y que dice que además es porque he criticado algunos operativos concretos

cuestión de meras fobias o filias de este parlamentario de lo que me gusta de lo que no me gusta de cuáles son mis gustos cuáles son mis preferencias para

pero yo sí que les quiero preguntar es suya la ertzaintza la pagan de su bolsillo

puedo recurrir a ella si me pasa algo es decir es un servicio público al cual yo pagando los impuestos puedo acogerme puedo acceder me lo

me lo van a impedir cuál es la cuestión no me gusta la ertzaintza dicen no me gusta esta ertzaintza señor prieto eta señor iturrate no me gusta cómo se gestiona la ertzaintza

no me gusta cómo tienen determinados

las funciones y los recursos los humanos y los económicos claro que creo que debe haber un servicio de seguridad público claro que creo

no tengo confianza en este por cómo se está gestionando por la forma en que se está dirigiendo por cuál es el encaje legal que se le quiere dar

otra cosa distinta creo que se debe de transformar este modelo pero ni siquiera se reforma más allá de lo anecdótico más allá de lo cosmético lo que estoy denunciando me dice el señor que no tengo derecho a veto claro que no somos dieciocho escaños pero tendré derecho por lo menos a tener mi propia posición política con respecto a la ertzaintza

el señor iturrate me concede ese derecho iturrate jaunak ere ematen du

y precisamente para qué cambiar y pensaba y si no lo ha hecho hasta ahora igual lo hace en el último turno que me va a sacar este informe de índice de desarrollo de organización para la cooperación y el desarrollo económico

que les da a ustedes parece ser un diez en seguridad bueno no hay nada más de lo que hablar no sé si es autocomplacencia o complacencia

este tipo de organizaciones que le da un diez en seguridad no al departamento de seguridad pero que el único

homicidios cero coma tres que es precisamente en lo que se basa este índice y seguramente

cómo debe ser este sistema de seguridad y cuáles son

precisamente se quedan con eso un diez para seguridad

algo que además en este mismo informe no pasa con un aprobado en cuestiones como ingreso per cápita en participación social o en políticas de empleo

que es poner todos los recursos humanos todos los recursos económicos a favor de la seguridad y desatender otros ámbitos de gobierno

tomar decisiones en base a necesidades que son infinitas pero recursos que siempre son finitos hautapen bateratuari ere

a quién apoyará esta reforma sin reforma efectivamente pp pse pnv curioso trío incorporando al pp que además de haber traído en los últimos tiempos las demandas más corporativas de los sindicatos y que tantas veces han chocado además con la consejería

convierten en compañeros buena sintonía con el pnv y pse nos había dicho ayer mismo la señora llanos

para la tramitación que a partir de hoy se va a poner en marcha parece que también con el fin de poder incorporar al texto

la tramitación parlamentaria las enmiendas que ellos mismos han propuesto algunos sindicatos señor iturrate nos hablan ya de un preacuerdo de reconocimiento de la carrera judicial preacuerdo de erne esan con el pnv pse y pp

establecen ciertos niveles antigüedad no competencias profesionales no capacidades técnicas méritos que es lo que viene en la ley sino meramente antigüedad para aumentar sus

prestaciones retributivas en sus sueldos sin duda han hecho lo más fácil sin duda han hecho

sino lo más barato en términos políticos que es sin duda

el apoyo del pp por estas prebendas pero lo que creo que es lo menos práctico porque esta ley yo creo que se va a decantar más hacia las posiciones del pp es un reflejo de la sociedad la policía que tenemos hoy en día la ertzaintza que tenemos hoy en día es un espejo de esa sociedad lo será más

señores del pnv van a aprobar esta ley

al mando de guardias civiles y policías nacionales o ya está zanjado el asunto el otro día el señor erkoreka y el señor aitor esteban

no sé si ya lo tienen resuelto pero me da la impresión que con la intervención que ha hecho hoy el señor iturrate no solo cierra la puerta a

enmienda a la totalidad sino que también quiere cerrar la puerta a cualquier acuerdo parcial porque ahora efectivamente se presenta con una mayoría se encuentran cómodos y esta ley ya la tienen aprobada honestamente señor iturrate creía usted que podía llegar a un acuerdo con eh bildu en estos términos sobre la ertzaintza sin tocar absolutamente nada absoluto que cambie algo para que no cambie nada sin ningún esfuerzo de aproximación aprobatuko duzue lege hau

pregunta si existe un solo modelo de policía y si existe una sola forma de organizar la policía efectivamente no existe ni un solo modelo de policía ni una sola forma de organizar la policía hay muchos modelos

muchos sistemas de organización en el mundo lo que sí existe es una organización un modelo porque un servicio público de seguridad necesita un modelo y una organización eso sí existe

hacer preguntas en el aire que no lleguen a ningún sitio por eso le planteaba que

de insinuaciones y de aspectos que

el fondo del asunto se lo ha dicho el representante del pnv y se lo digo yo también se lo he dicho en mi primera intervención

la ertzaintza en sí misma no le gusta esta policía

y porque además usted ha estado permanentemente cuestionándola y ha estado permanentemente denostándola

los medios y los recursos para ejercer la función de seguridad que tiene por lo tanto como usted ha hecho todo eso ahora no hace falta interpretarle sino simplemente

a que es razonable que haya planteado una enmienda de totalidad el modelo se lo cuestionan muchos y es cierto pero hay que decir las verdades enteras es cierto que erne

en esta cámara a todos los grupos políticos donde hablaba del modelo

de ese documento al modelo policial pero a continuación

las propuestas concretas que como sindicato que defiende unos intereses concretos dentro de sus afiliados y del conjunto

quería plantear y efectivamente eso es un preámbulo pero no es un preámbulo de cuestionamiento a la ley de policía

de una introducción a una serie de aspectos concretos que por cierto hoy ya

no solamente de las enmiendas que hemos presentado el grupo nacionalistas vascos y socialistas vascos sino también de aportaciones que están en las enmiendas

esta reforma de la ley no es la reforma que originariamente sale de la consejería sino que es un proyecto de ley que tiene ya

aportaciones de las asociaciones aportaciones de los ayuntamientos aportaciones de los partidos políticos y yo me pregunto cuánto cuestionamiento

policial en el país vasco si resulta que tiene un importantísimo acuerdo sindical un determinado apoyo sindical un apoyo municipal un apoyo asociativo y un apoyo de una mayoría de grupos políticos cuál es el cuestionamiento al modelo oiga no conviertan sus obsesiones en problemas políticos de esta cámara

en algo de lo que no tenemos más remedio que responder

nuestro problema nuestros problemas son las demandas reales que se perciben desde la sociedad

mejorar para perfeccionar para atender mejor para servir mejor desde la función pública a la ciudadanía y ciertamente han llegado problemas de coordinación desde los ayuntamientos problemas de desarrollo de las funciones policiales

propios agentes en relación con sus condiciones laborales

también exigencias mayores de la sociedad y de las instituciones de aquí y de fuera de aquí e incluso las europeas

en la función policial y esas cosas son las que se van incorporando no se trata de responder a las obsesiones de un grupo político se trata de incorporar aquellas cosas que la propia sociedad va demandando y que en un momento determinado hay la suficiente madurez y la suficiente correlación de fuerzas para poder llevarla a la práctica y este es el modelo

ahora y esta es la organización es decir un modelo y una organización que tiene capacidad de mejora y que lo vamos a aprovechar y además con un alto consenso político social sindical para que se pueda llevar a efecto en este cámara obviamente si estuviéramos satisfechos

y estuviéramos satisfechos del todo con la organización policial no habríamos traído aquí un proyecto de ley para reformarlo y no le estaríamos incorporando modificaciones porque ante la satisfacción no cabe estar perdiendo el tiempo dos cosas más muy brevemente presidenta

señor arzuaga si la ertzaintza es particular

esta pregunta yo diría que es un tanto inoportuna en este momento de la semana porque su grupo pidió amparo a la mesa de este parlamento pidió amparo al gobierno de este parlamento y

unas amenazas o supuestas amenazas que se han planteado ante usted sino que además y dijo al jefe de seguridad

se pusiera a su disposición para atenderle si necesitaba algún tipo de protección para evaluar lo sucedido en fin para todo lo correspondiente

suya que cuando la pide ahí la tiene para lo que la necesite y termino solamente con

desde el punto de vista político es realmente la importante la seguridad

es también una cuestión subjetiva para que esa parte subjetiva se pueda desarrollar es necesario que

y que quienes tienen la responsabilidad pública de organizar ese servicio la responsabilidad política de organizar

sean creíbles tengan una hoja de servicios intachable para poder hacerlo hayan defendido los derechos humanos en todas las circunstancias

tiene esa asignatura pendiente a mí me da igual si la aprueba o no porque ese es su problema pero

esto y por lo tanto desde luego a la seguridad subjetiva para la seguridad subjetiva

y su grupo está totalmente inhabilitado y para la seguridad objetiva

presidente andrea señor arzuaga preguntaba solemnemente

la ertzaintza es nuestra si nos pertenece pues no ya sabe usted que no

nace de este pueblo de sus instituciones legítimas representativas y nace para servir a este pueblo lo que sí

lo que sí estamos comprometidos desde su fundación porque la impulsamos en mejorar en trabajar

en la defensa de la ertzaintza en los peores momentos cuando

o se les quemaba vivos en sus furgonetas por supuesto la ertzaintza no es patrimonio del pnv pero el pnv está firmemente comprometido desde el inicio con la

policía civil como policía comprometida con los derechos humanos

orgullosos siempre e intentando su mejora ojalá

puede recurrir usted a sus servicios por supuesto ya lo sabe además y lo ha hecho y lo ha hecho recientemente por lo tanto preguntas retóricas menos

mire vuelve a acusarnos de autocomplacencia y saca un informe

aludió en comisión de la ocde que nos sitúa con un diez en seguridad

no es de sabin etxea no lo ha hecho joseba aurrekoetxea si lo hubiese hecho el

si nos hubiese calificado con un cuatro con un tres hubiese

al gobierno de ineficacia de falta de compromiso con la seguridad como da un diez y lo mencionamos somos autocomplacientes en fin en todo caso será mejor eso que el modelo que usted plantea el escocés al que ha hecho referencia cuando

ciudades europeas con mayor índice de criminalidad por ejemplo no sé revise un poco lo de la autocomplacencia lo del manual de palabras reiteradas que sirven para todo mire respecto a la academia de arkaute es que

tienen su opinión y sus obsesiones y es que sus obsesiones es

ustedes tienen obsesiones con la ertzaintza y con arkaute y con todo lo que rodeo y claro a ustedes les parece mal que los ayuntamientos voluntariamente recurran a la academia de arkaute para realizar los procesos

pero no les parece mal que las policías municipales que los ayuntamientos recurran al ivap que también es

para hacer el mismo trabajo es que el problema no es la legitimidad no se la da el que se recurra o no sino si quien recurre si quien hace la selección ese proceso formativo es un alcalde de euskal herria bildu

para hacerlo con el ivap y no si lo hacen todos los demás mire ya

volver a insistir otra vez en la falta de legitimidad de los grupos que apoyamos al gobierno de negociar con el partido popular la reforma de la ley de policía

es que hace falta mucho valor o sea resulta que

que hoy le viene bien plantear como los representantes de jusapol en el parlamento y que al parecer ensucian todo lo que tocan y por lo tanto si pactamos con ellos esta ley queda calificada como un ejemplo de ley

esos votos no sirven para aprobar la ley pero sí sirven para devolver el proyecto porque es que usted

habló con el partido popular antes para garantizar que el proyecto se devolvía usted propuso al partido popular una estrategia específica de trocear la ley por si ellos no estaban en disposición de si no les venía bien pues estaban dispuestos ustedes a trocear para que una ley

las mejoras a los agentes de la policía pudiese tener curso y en lo demás vamos a darle garrote al gobierno para eso sí valen los amigos de jusapol mire usted por mucha

impostura por mucha exageración por mucho griterío que realice usted aquí usted con esos señores a quienes ha despreciado

con esos señores intentó negociar hasta el extremo de proponer trocear la ley para que fuese devuelva al gobierno para poner infligir una derrota al gobierno mire

sí rotundamente sí y si lo va a ser más con esta ley por supuesto que sí rotundamente sí mucho más porque va a tener más controles y más transparencia

porque va a promover más la normalización lingüística entre otras muchas razones pero ustedes quieren evitar

hasta ahora y que siga mejorando ese prestigio porque como les he dicho al final de mi intervención en su historia

en ustedes es hora de que se la sacudan ya nada más eskerrik asko iturrate jauna

gracias señora presidenta buenos días a todos la verdad es que sin haber intervenido todavía

el partido popular ha sido el eje de este debate bien antes de nada y de empezar a intervenir quiero dar la bienvenida a los sindicatos de la ertzaintza que están hoy aquí para nuestro grupo son bienvenidos para nuestro grupo su presencia no es objeto de provocación sino de satisfacción porque están en su casa mi reconocimiento también a todas las fuerzas de seguridad a todas ellas pero que hoy centro en quienes están aquí gracias a todos los sindicatos de la ertzaintza a erne a esan a euspel a sipe

a los sindicatos de la policía local a la asociación de alguaciles a todos los agentes que nos han ayudado tanto en las comparecencias como en reuniones que hemos tenido

sobre todo quiero darles las gracias por su trabajo diario en defensa de

por su trabajo en garantizar el orden público y la seguridad porque esa seguridad

esa seguridad en abstracto no existe esa seguridad tiene nombre y apellidos esa seguridad

que están en la calle sufriendo a veces agresiones sufriendo mucho para dar seguridad a la ciudadanía porque sin agentes

no existiría la seguridad desde el partido popular estamos muy agradecidos a todas las fuerzas a la ertzaintza a la policía local a los alguaciles y creo

nadie puede dudar del compromiso del partido popular

nadie hemos votado que no a las enmiendas de la totalidad por varios motivos en primer lugar porque queremos

porque consideramos que la modificación de la ley es necesaria que es necesaria esta quinta modificación de la ley de policía es una modificación que como se ha dicho aquí se ha intentado

en muchas en varias legislaturas y que no ha sido posible por distintos motivos pero que en todas ellas nosotros hemos considerado que era necesaria la reforma no cualquier reforma y por eso hemos presentado enmiendas pero sí que era necesario la ley pero además también no solo nosotros consideramos que es necesaria la ley democracia la democracia

la democracia es escuchar a la ciudadanía y en este caso escuchar a los que más afectados están por esta ley y a todos ellos o prácticamente todos ellos

quieren que esta ley salga adelante no quieren que esta ley se devuelva pero no solamente como se ha dicho aquí o como se pone

introduce una serie de cuestiones que es necesario que se pongan al día y es necesario que se pongan al días aspectos que se consideran

quieren que se vuelva atrás la ley para en teoría presentar una ley nueva completa que además a nuestro juicio no ser necesario

también hemos votado en contra por el contenido de las propias enmiendas a la totalidad porque en las enmiendas a la totalidad se habla del modelo nosotros estamos de acuerdo con el modelo de lo que es nuestra policía una policía cercana una policía próxima una policía constitucional y estatutariamente

la defensa de los derechos y libertades y para ello para ello y cuando sea necesario

algunos no pretenden que haya policía no sé lo que pretenden pero la policía no no les gusta y no les gusta la ertzaintza y pretenden un modelo que nada tiene que ver cosa bien distinta es la aplicación de ese modelo que es a lo que yo creo

en que la aplicación del modelo la organización policial sujeta a ese modelo es muy mejorable lo hemos dicho en muchas ocasiones lo hemos denunciado en muchas ocasiones y lo seguiremos haciendo

necesario se pretenden incluir por parte de en la enmienda de eh bildu cuestiones que no son objeto de la misma como los ratios las tácticas las intervenciones

la regulación de la seguridad pública cuando está regulada en una ley paralela que si se quiere reformar habrá que proponer su reforma pero sin tener porque incluirla en esta ley de policía y luego dentro de la enmienda de eh bildu sí este grupo también lo tiene que decir y por eso hemos votado en contra

claramente esas obsesiones enfermizas y esa animadversión que los proponentes tienen sobre la ertzaintza y sobre el resto de fuerzas de seguridad del estado porque hablan en la enmienda la ley debiera de hablar del repliegue de la policía nacional y la guardia civil ni puede ni debe porque ambos cuerpos están aquí por derecho propio porque cumplen funciones que constitucionalmente

que nosotros también tenemos propuestas para modificarla pero lo que quiere es deslizar esa idea esa idea

de la tortura de que nuestra policía tortura pues tengo que decir que ni una sola condena ni una sola condena

quince ertzainas han sido asesinados han sido objeto de veintisiete atentados y han sido objeto de mil trescientos acciones de kale borroka han sufrido como ander susaeta palizas solamente por el hecho

o han visto como se intentaba quemar vivos como

viene a dejar veladamente que han torturado todavía no ha condenado ni uno ni uno de esos actos claramente con su enmienda

esa animadversión que siempre ha tenido a la ertzaintza eh bildu sigue con ella y con relación a podemos

que una enmienda con ese concepto que usted aquí también hoy ha deslizado de seguridad humana y también viene a decir que

siquiera a cuáles serían las características de ese modelo

hemos dicho como décimos la ley tiene que seguir su trámite incluye aspectos importantes que tienen que ser modificados que tienen que ser puestos al día no solo la carrera profesional léanse nuestras cincuenta y siete enmiendas parciales y verán que no solamente incluye la carrera profesional pero la carrera profesional también

qué pasa que cuando se defiende al resto de los funcionarios se nos llena la boca de los derechos del derecho a la carrera profesional de los funcionarios de sus remuneraciones porque nosotros aquí hemos recibido a otros sindicatos que no están presentes en la ertzaintza que nos hablan de las reivindicaciones qué pasa

a tener reivindicaciones laborales no son trabajadores son trabajadores exactamente igual que el resto y por eso también tienen sus derechos que sean reconocidos y por eso que en esta ley se reconozca la carrera profesional que no solo tiene en cuenta la antigüedad sino también otras cuestiones me parece totalmente adecuado

el partido nacionalista vasco y el partido socialista con los que sí hemos hablado porque nosotros hemos buscado el acuerdo porque

muestra disposición de acuerdo y nosotros desde el primer momento cuando hablamos con el partido nacionalista y cuando hablamos con el partido socialista le dijimos que nosotros estábamos dispuestos al acuerdo para sacar adelante esta ley nosotros eso es acordar eso es acordar por qué

porque nosotros somos un partido responsable que pone los intereses de la ciudadanía por delante

a nuestro juicio hubiera sido mucho menos responsable porque creo que ahora que empieza el debate entre todos debemos conseguir una ley que esté a la altura de los profesionales

de orden del día ha sido a petición de nuestro grupo por una reunión importante

a dirigir a las señoras y señores parlamentarios con la cuestión que traemos a debate que es una cuestión sencilla

o república ese es el debate que planteamos hoy al parlamento vasco cuando apenas faltan como saben ustedes tres días para el catorce de abril aniversario de la proclamación de la

tres días para el aniversario de la proclamación de aquel democrático que trajera tantos avances para la sociedad en materias de igualdad educación cultura justicia social y también en materia de autogobierno entre otras cuestiones tres días para el aniversario de la proclamación de aquel imperfecto régimen democrático que fue cercenado posteriormente mediante el golpe

pero sobre todo traemos el debate monarquía o república en un momento de crisis modelo monárquico existente desde mil novecientos setenta y ocho no pretendemos hoy discutir de la

de la transición lo que pretendemos debatir es una cuestión elemental

o república un debate entre los dos modelos de estado posibles y sobre los cuales la ciudadanía vasca tiene opinión

manifestarse pretendemos hablar de monarquía o república una cuestión sencilla y sin mucho lugar para las equidistancias

no hay más los tiempos de aquella frase que conocerán ustedes no soy monárquico pero soy juancarlista ya desaparecieron afortunadamente desaparecieron enterrados por la propia conducta del rey emérito

ni con el trato de favor por parte de la mayoría de la prensa durante décadas consiguió esconder su comportamiento inaceptable sus negocios manchados de sangre sus cacerías ostentosas y su claro posicionamiento en el tablero político al servicio de la oligarquía y de sus propios intereses particulares

cuando la pieza ya no se sostenía en pie para sustituirlo por felipe por su hijo necesario lavado de cara para salvar una monarquía cada vez más impopular inútil e incluso corrompida se trataba de salvar una institución clave para el mantenimiento del estatus quo de las élites económicas y políticas para que nada

sus privilegios y eso pasaba por mantener la forma de estado monárquica una fórmula

autoperpetuar en el tiempo sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía y por lo tanto una fórmula en nuestra opinión antidemocrática pero ningún pueblo ni el nuestro ni ninguno otro necesitan ser tutelados por alguien al que nadie ha elegido

queremos participar en la elección democrática de todos y todas nuestros representantes democracia es decidir también la forma del estado y la jefatura

de ello no tiene sentido que en pleno siglo veintiuno la jefatura del estado se herede por fecundación sin responder a ningún criterio democrático pedimos algo tan sencillo como que la máxima institución del estado se elija democráticamente mediante sufragio universal así de simple esta apuesta la hacemos desde el convencimiento de nuestros valores republicanos

no es solo una forma de estado más democrática que lo es también es una forma más profunda de entender la democracia desde los valores cívicos la conciencia crítica la participación ciudadana y los derechos sociales

es un nuevo modelo más justo más democrático y más igualitario en el que se cumplan los derechos humanos y los pueblos sean realmente soberanos protagonistas de su propio destino

es sinónimo de pasado y de tutela la república es sinónimo de futuro y de democracia este principio elemental la república como fórmula democrática de estado donde todos los representantes públicos deben ser elegidos democráticamente con el voto popular

no de ley estamos convencidos y convencidas de que la mayoría del pueblo vasco la mayoría de la ciudadanía de euskadi respalda sin dudar esta declaración

del parlamento vasco nosotros nos hubiéramos conformado nos conformaríamos de hecho con que se aprobase este principio tan elemental en nuestra opinión que debería ser respaldado por esas mayorías amplias de las que tanto oímos hablar en ocasiones

preguntamos es qué acaso no hay una amplísima mayoría en este parlamento que respalda este principio democrático principio que

rechazado por el mismo parlamento no ha habido en ningún grupo parlamentario la más mínima intención de intentar llegar a un acuerdo sobre esta cuestión en nuestra opinión tan básica nos unen valores republicanos a una amplia mayoría de esta cámara estoy seguro que los portavoces de la mayoría

y sin embargo ningún grupo le ha cogido el guante a la coalición que represento para que este parlamento aprobase hoy un texto en el que plasmar esos valores republicanos aunque fuera un acuerdo de mínimos nosotros desde luego lo hemos intentado sabemos que defendemos

diversos y sabemos que defendemos vías diversas para llegar a esos modelos republicanos por esa razón nuestro grupo no ha traído una iniciativa

elkarrekin podemos yo hoy no he venido a hablarles y no lo hace nuestra iniciativa de la tercera república social y plurinacional

socialista que yo anhelo y por la que yo peleo somos conscientes y soy muy consciente de que eso imposibilitaría los acuerdos amplios en este parlamento no hemos sido maximalistas para dejar contenta a nuestra parroquia todo lo contrario hemos planteado hemos traído al parlamento una iniciativa de mínimos democráticos perfectamente respaldable en nuestra opinión por la mayoría de grupos de la cámara y hemos mostrado además nuestra disposición a negociarla con todas las enmiendas a la totalidad planteadas

similar por parte de la mayoría de grupos nos venían a decir no tenemos nada en contra de vuestra iniciativa pero no vamos a llegar a un acuerdo es lo que me han dicho con diferentes expresiones la mayoría de portavoces parlamentarios

que una iniciativa que no genera especial rechazo de salida no pueda ser la base para llegar a un acuerdo cuando en otras materias partiendo de puntos

de mínimos pensamos que nadie ha querido llegar a un acuerdo y lo lamentamos no querer llegar a un acuerdo en una cuestión

monárquico la petición de igualdad ante la ley de toda persona

que ocupe la exigencia de rendición de cuentas ante el legislativo por parte de la institución que ostenta actualmente la jefatura del estado y la supresión

monárquica por lo tanto pensamos que se puede perder una oportunidad

manifestarnos como parlamento sobre estas cuestiones de democracia elemental de la misma manera que pensamos que hubiera sido oportuno aprobar la realización de un sociómetro específico sobre la percepción de la ciudadanía vasca sobre la casa real la jefatura del estado y el propio modelo de estado

sobre estas cuestiones y sin embargo esta cuestión tampoco

yo les ofrezco a los grupos con los que no he conseguido llegar a un acuerdo la votación por puntos yo lo dejo ahí

al igual que nos gustaría saber su opinión sobre el resto de puntos de nuestra iniciativa en los que planteamos la necesidad de que los presuntos delitos que afectan a la monarquía puedan ser investigados en los tribunales y fiscalizados por el poder legislativo es una cuestión en nuestra opinión también de principios democráticos elementales

ante la ley no todos y todas somos iguales ante la ley bajo esta monarquía y eso no se puede permitir en un estado democrático

en los últimos años y meses han sido múltiples las noticias sobre escándalos corrupción y malos ejercicios del papel institucional por parte de la monarquía y la jefatura del estado

las cacerías en botswana la actuación del ex jefe de la casa real

institución por esa razón entre otras la ciudadanía está manifestando un creciente desapego por ella y exige que dejen de gozar de una especial protección especialmente cuando se trata de rendir cuentas ante la justicia

para dar protección a amistades de juan carlos de borbón además de ocultar o hacer desaparecer documentos probatorios que ponen de manifiesto actividades particulares del anterior jefe del estado y sus socios cuya finalidad era el cobro de supuestas comisiones

esta es la monarquía realmente existente en nuestro país y a la que no podemos someter con garantías al dictado de la justicia ni al control democrático

el código penal ofrece más protección a la casa real que a cualquier otra institución o ciudadano del estado a través del delito por ejemplo de injurias a la corona aspecto que ha sido cuestionado varias veces por la justicia europea que considera que los ordenamientos

a sus cargos instituciones más importantes al contrario deben permitir un amplio grado de crítica por tratarse de instituciones públicas sujetas al cuestionamiento

en esos términos se expresó el propio tribunal europeo de derechos humanos el año pasado cuando dictó una sentencia en la que consideraba que la audiencia nacional y el tribunal constitucional vulneraban el artículo diez de la convención de derechos humanos al sancionar una expresión simbólica de crítica legítima a la monarquía

y la monarquía no puede ser una excepción y en este país sucede se coarta la crítica política y se persigue a quienes simplemente hacen gestos o actos simbólicos de rechazo a la monarquía entre ellos

ha sido objeto de controversia el propio desempeño de las funciones de jefatura del estado y es que momentos de grabe crisis institucional social y territorial como el que estamos viviendo

al entendimiento todo lo contrario al actual actuación del jefe

más propia de un incendiario que de un bombero esa es también la monarquía realmente existente cuyo papel desde luego dista mucho de aquel que el pnv propone en su enmienda a la totalidad a nuestra iniciativa donde los jeltzales vienen a decir que aceptarían la monarquía española

al estado con el autogobierno vasco realmente necesitamos un monarca al que nadie puede elegir en votaciones para eso señor latxaga creo que no y creo que usted cree que no por eso no comparto en absoluto

en resumen el fin que inspira esta iniciativa era abrir de forma constructiva un debate político sobre una cuestión básica sobre cómo entender la democracia

a la crítica porque son expresiones de problemas reales y objetivos de la actual jefatura del estado

de nuestra comunidad para mí el mero hecho de poder discutir en este parlamento sobre esta cuestión y que los grupos se posicionen al respecto

porque creo que somos cientos de miles las y los republicanos que queremos escuchar a las y los representantes políticos hablar de república también en las instituciones pero lamento en cambio que ningún grupo haya sido capaz de intentar anteponer

que nos unen por encima de sus objetivos políticos concretos o de sus modelos concretos como decía anteriormente nosotros no veníamos hoy aquí a exponer

y no lo dice nuestra iniciativa nosotros no veníamos aquí hoy a decir gora hirugarrena

nosotros hoy aquí nos conformábamos con un acuerdo republicano de mínimos para poder decir eso sí gora errepublica

pero tengo un proceso gripal así que lo procuraré hacer con calma y con sosiego

lleva por enunciado el compromiso del parlamento vasco con los valores republicanos y la democracia

aunque de lo que se pretende discutir aquí no es de eso sino de una propuesta para cambiar la constitución algo que todos los partidos que estamos representados aquí podemos plantear si se quiere en las cortes generales donde algunos conseguimos abrir incluso en la legislatura recién acabada un foro para esa discusión pero con la que todo el mundo

donde no lo podemos hacer pero bueno todo el mundo tendrá oportunidad de que pasado este desahogo de hoy se trabajen las cosas donde se deben de trabajar que es en este caso en el congreso de los diputados

va de monarquía y en este caso como republicano y socialista soy también demócrata

admitir la pluralidad de un país las distintas formas que se plantean para organizarse y respetar los pactos que se alcanzan

de sentirse ciudadano y como demócratas convencidos y como herederos de los valores republicanos los socialistas asumimos el gran acuerdo que hizo posible

y también la de mayor descentralización que hayamos vivido nunca en euskadi y en el conjunto de españa y ese acuerdo constitucional determina entre otras muchas cosas

y esa decisión ese acuerdo no fue precisamente socialista la monarquía tal como está recogido en todos los datos históricos

del partido comunista con el aval imprescindible del nacionalismo vasco y catalán y con el criterio concreto

fíjese usted pero una vez que esa restauración forma parte del acuerdo de convivencia el partido socialista se puso a la vanguardia de la defensa de ese gran pacto y a lo que parece es que lo sigue salvaguardando frente a quienes se empeñan en anularlo desde el desprecio

desde los independentismos o desde las derechas otra cosa es que hablemos de la impunidad de los delitos que se pudieran cometer desde el ejercicio de cualquier poder político sea la corona o sea desde cualquier otra instancia o de que el poder público sea la corono o cualquier otra instancia tengan un escudo

algo que deberá ser corregido en el código penal código que por cierto se modifica también en las cortes y no desde el parlamento

y a ella nos vamos a ceñir porque la iniciativa que se nos plantea hoy nos parece que busca más que alguien se redima de su pasado de su propia memoria histórica sobre su papel

como ya nos explicó el señor hernández en el debate que tuvimos a finales del año pasado sobre el aniversario de la constitución el partido comunista ya renegó de todo en su momento y ahora está en otra cosa los socialistas seguiremos reivindicando mientras tanto

que tuvieron quienes lo perdieron todo después del golpe de estado del treinta y seis la guerra civil y las cuatro décadas de represión franquista la gran visión de socialistas comunistas y nacionalistas que supieron ver la oportunidad de recuperar las libertades perdidas

inmenso de generosidad que seguimos reivindicando mi grupo echa en falta esa visión en estos tiempos que corren echamos en falta una mirada realista

a base de ponerse de acuerdo entre diferentes se están poniendo en peligro y cuando los socialistas hablamos de reforma constitucional no queremos discutirnos nada más en discutir la forma de la jefatura de estado nos parece mucho más urgente

para que ningún gobierno al calor de ninguna mayoría coyuntural pueda cambiar el sentido de lo previsto en el artículo cincuenta nos parece más urgente pensar en el blindaje

no en un mera declaración sobre la no discriminación por razón de sexo

blindar el derecho a la vivienda que es un principio rector y que en euskadi hemos conseguido transformar en derecho subjetivo con la voluntad expresa de hacer realidad ese principio rector del artículo cuarenta y siete fíjese usted estoy nombrando esos artículos de la constitución

pero hay quienes prefieren trocear el debate sobre una reforma constitucional

u olvidando expresamente el valor del pacto conjunto fue por lo que el psoe que se mostró contrario inicialmente apoyó el texto por su valor global no solo porque no nos satisfaga más uno u otro apartado y eso para nosotros sigue teniendo valor

en la consecución de aquel gran acuerdo del que ahora parece que reniegan los herederos de la pasionaria o de alberti que formaban parte de aquellas cortes constituyentes que en el setenta y siete aplaudían llenos de esperanza cuando el rey entró en el congreso ustedes sus antecesores

que si la monarquía no obstaculizaba el autogobierno la forma de estado era secundaria como señalaba entonces el pnv no sé porque luego y a raíz de esta misma iniciativa que debatimos hoy el pnv no pidió

ni en el de vitoria pero sí lo hizo en las juntas generales de bizkaia y hoy parece que lo pueden hacer también

en vitoria en este parlamento y en el congreso de los diputados coherentes con el valor de la constitución como inmenso pacto de convivencia entre ciudadanos españoles y entre territorios y coherentes con que se pueda reformar con consenso

en todos los ámbitos en todos no solo en este al menos como los que quienes nos dejaron este país democrático lograron hace cuatro décadas por eso
no vamos a apoyar su propuesta aunque estaríamos dispuestos a admitir esa votación por puntos que usted planteaba eskerrik asko pastor jauna

sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi como ha dicho el señor hernández no negamos que tengamos muchas coincidencias algunas coincidencias con sus planteamientos en este debate se dirimen dos cuestiones bien diferentes entre sí

y de su iniciativa se desprende un doble debate bien diferente a nuestro juicio y a mi juicio en primer lugar la existencia misma de la monarquía

de la propia institución y la protección jurídica de la que goza en el ordenamiento jurídico y luego hay una segunda cuestión

que incide en cuál debe ser el comportamiento del rey como jefe de estado cuáles son sus derechos y sus obligaciones

dando por buena o válida la situación actual tal cual en resumen es una cuestión o hay dos cuestiones aquí a dirimir

y otra diríamos de transparencia de la primera cuestión habría mucho que hablar y no es cuestión de adentrarnos en un debate histórico para el que no gozamos de tiempo suficiente en esta cámara aunque la verdad también sea dicho que la cercanía a la fecha del catorce de abril también invita a hacer

histórica pero lo cierto es que a nuestro juicio el pacto constitucional de mil novecientos setenta y ocho

pero mucho más de imposición el señor pastor ha aludido antes a la generosidad del pacto constitucional para nosotros no fue

en aquel acuerdo hubo algunas materias no sujetas a discusión no sujetas a discusión materias directamente impuestas desde el mantenimiento

y funcionarios que habían participado en la represión del régimen hasta la propia forma del gobierno la indiscutible indiscutida

se realizó el pacto llamado constitucional que fue refrendado por la ciudadanía en un pack un conjunto indisoluble e indiscutible la monarquía como ha dicho también el señor urizar señalada por el dictador como

quedaba acomodada y sobre todo insertada en los nuevos tiempos a través de aquel pacto esta nunca pudo ser verdaderamente cuestionada porque formaba parte de ese paquete a preservar que tenía su origen en el viejo

así fue imposible entrar en una discusión auténtica sobre la forma de gobierno una república nunca hubiera

eso creo que es algo que el común de los mortales hoy en día lo puede reconocer beraz espainiar estatuaren

que tuvo en el año setenta y ocho el pnv entiende que hoy al igual que entonces no se siente comprometido con el apoyo al marco constitucional aprobado en el estado que incluye obviamente la monarquía cosa bien distinta es que

por imperativo legal las reglas del juego en él dispuestas si los poderes del estado

que demos nuestra aquiescencia a la forma de gobierno deberá renegociarse el conjunto de la constitución discutir y abordar el propio modelo de estado

o a la pregunta que me planteaba el propio señor hernández beraz berrogei urte igarota are handiagoa da eredu

el partido nacionalista vasco es republicano lo lleva

el partido nacionalista vasco por otra parte es un partido exclusivamente vasco euskadi es nuestra

nuestro compromiso nuestro inicio y nuestro fin no forma parte de nuestras prioridades políticas la forma del estado que se adopte en españa con eso también creo que le contesto

de alguna forma alegaba el señor hernández de alguna forma quiero repetirlo no forma parte de la prioridad del partido nacionalista vasco la forma de estado que se adopte en españa

en nuestro ideario solamente se contempla que la representación política legitimada es la dimanada de la voluntad popular es decir la expresada

en tal concepto no encuentra amparo la sucesión dinástica luego conceptualmente el pnv no es un partido monárquico
sino isiltasuna mesedez sino republicano hogeita bat

en el siglo veintiuno parece de recibo que la república sea la forma de estado más acorde con los tiempos un sistema en que los ciudadanos y ciudadanas elijan periódicamente

en el que viven beste alde batetik eta bigarren

sobrevenido y coyuntural influido sin ninguna duda por la falta de ejemplaridad de la monarquía que dio lugar

del anterior monarca tiene que ver con esos escándalos sonados que se han mencionado aquí

la institución monárquica deberá estar basada en la transparencia no solo de su actividad pública sino de las finanzas de la casa real y su patrimonio personal

tampoco es comprensible para la ciudadanía que el jefe del estado no responda penal

su inviolabilidad por la jurisprudencia por las acciones personales que haya realizado en el ámbito privado no parece que sea verdad

de que la justicia sea igual para todos horretan ados gaude elkarrekin podemos bere ekimenean esaten dituen hainbat gauzekin

al albur de las intervenciones de los diferentes parlamentarios y espero que a pesar de las numerosas notas pueda mantener este compromiso previo más allá de la argumentación política

en esta cámara incluso en este periodo de sesiones yo me he quedado con dos ideas que me parecen relevantes la primera de ellas

intervención del señor hernández cuando se ha manifestado satisfecho porque ya el mero hecho de provocar este debate le satisfacía y en vísperas

escaño o estamos al lado valores republicanos realmente si los valores republicanos de referencia a los que usted alude continuamente no les da contenido pero esos valores de referencia

son los de libertad igualdad y fraternidad esto podría ser un espacio común en el que podríamos compartir todos

es una monarquía parlamentaria de corte republicano porque esos valores republicanos están consagrados

cuando define nuestro modelo de estado como estado social democrático y de derecho y quizás es una adecuación al siglo veinte ya al siglo veintiuno

de hace siglos también tranquiliza señor hernández

esta moción y esto no es una crítica sino es una descripción de la realidad

por el contexto electoral que por la necesidad de debatir sobre una monarquía o sobre un sistema parlamentario

y a ninguno de los que estamos aquí ni tan siquiera a estos señores de bildu y mucho menos a los de podemos

porque la realidad es que si nos ponemos

sobre la naturaleza de nuestro sistema y de la monarquía en concreto podemos convenir que el jefe del estado

no tiene esa potestad el jefe del estado no tiene la potestad para nombrar por ejemplo al presidente del gobierno

el jefe del estado no tiene la potestad ni el derecho de veto por ejemplo a ninguna iniciativa legislativa a efectos prácticos

formales y de fondo la jefatura del estado en españa

ejerce una función meramente simbólica extraordinariamente importante sin duda

o amenazado en muchos de sus símbolos que nos unen a todos y que ejemplifican este sistema de convivencia en democracia

yo me pregunto en numerosas ocasiones porque créame que esta es una reflexión que uno se hace porque tiene vocación

nuestro modelo de convivencia un cambio de modelo por ejemplo un modelo republicano honestamente me lo planteo en muchas ocasiones las ventajas

nuestra convivencia para la capacidad de acuerdo y no le encuentro creo más bien que dificultaría la gobernabilidad que dificultaría el encuentro y que provocaría probablemente choques y bloqueos

yo me planteo si tuviéramos un jefe del estado incluso entre partidos del mismo color si tuviéramos un jefe del estado por ejemplo que fuera

y que dificultaría mucho la adopción de acuerdos si el debate es doctrinal si el debate es doctrinal comparto con usted y con algún otro que ha intervenido aquí que quizás el carácter hereditario

y vitalicio de la institución admite un debate con ciertas grietas

pero si el debate es político si el debate es político de fondo y es serio la monarquía constitucional nuestro sistema parlamentario

la monarquía es un sistema que ha otorgado estabilidad innegable una representatividad que aunque a algunos les guste o a otros no nos representa a todos y con eficiencia y eficacia

por personas que forman parte de los partidos políticos que hoy han criticado porque el señor latxaga decía una cosa que me ha resultado sorprendente

la monarquía los derechos históricos son anacrónicos

por el hecho de que su origen sea casi medieval porque fueran sancionados por el señor de bizkaia

de verdad que esto es el partido nacionalista vasco está copiando los argumentos de ciudadanos de verdad que los derechos históricos también

en la ponencia de autogobierno luego la realidad

la realidad es que hay monarquías que son plenamente democráticas además de la española está holanda noruega suecia reino unido y hay repúblicas que son todo lo contrario a regímenes democráticos

venezuela y corea del norte por ejemplo ya entiendo que a algunos les puede gustar más venezuela señor hernández no voy a entrar en corea del norte por no hacer demasiada sangre

mucho más venezuela que el reino unido que holanda que suecia que noruega o que españa

y que garantiza la unidad de la nación es verdad eso simboliza también pero no solo simboliza la unidad de la nación simboliza ese estado social y democrático de derecho

de la igualdad de la libertad y la fraternidad consagrados en los valores republicanos de la revolución francesa por lo tanto yo creo que aquí

no es ante un debate sobre la utilidad sobre el anacronismo modernidad su carácter democrático o antidemocráticos sino que estamos ante un intento de poner en cuestión

tan legítimo como que otros nos opongamos de poner en cuestión un modelo un sistema

el mayor progreso la mayor estabilidad la mayor modernización como nunca en nuestra historia como nunca en la historia de españa y también en la historia de euskadi un sistema y un modelo que permite que por ejemplo hoy estemos debatiendo aquí y que usted pueda venir a esta tribuna

situación que no se produce y que no se permite en algunas otras repúblicas por muy repúblicas que se llaman y la monarquía parlamentaria pervivirá en tanto en cuanto sea útil y en tanto en cuanto

como bien sabían entre otros unos viejas comunistas hoy puestos en tela de juicio por los comunistas new age postmodernos viejos comunistas

junto con otros viejos comunistas de entender que este modelo es el que españa necesitaba y que garantizaba esa convivencia y el que hoy cuarenta años después

si dije en mi anterior intervención que no pretendíamos hoy venir a hablar

de la transición y al señor pastor ya le explique en una anterior ocasión al hilo de un debate que no trajimos nosotros sobre el aniversario de la constitución cuál es el posicionamiento actual desde hace muchos años no actual de hace tres días del partido comunista sobre un acuerdo que efectivamente yo dije aquí que nosotros

que tuvo una parte de acto de generosidad pero creo que una parte de acto de generosidad producto de la correlación de fuerzas que había

aquella correlación de fuerzas es la que hizo que algunos partidos no solo el mío firmasen aquel pacto constitucional que por cierto como ya dije ha venido rompiéndose a lo largo del tiempo porque las cuestiones

de aquel pacto no se han cumplido y esa es la razón legítima por la que mi partido que no es quien habla hoy aquí porque vengo en representación de una coalición más amplia

aquel pacto y no se trata como ya dije de enmendar la plana a lo que se hizo entonces o no por eso no queríamos hablar nosotros

y tengo mi opinión sobre el resultado de aquel proceso y no tengo una varita mágica para saber si hubiera sido posible un resultado diferente lo que sí

he sentido profundo respeto por quienes entre comillas

aquel marrón porque es muy fácil decir se equivocaron o lo hicieron mal pero para ello había que haber estado allí y yo no estaba

pero ustedes varios portavoces creo que han hablado de

ni hemos hablado de la república española no habla nuestra iniciativa de la república española

para el conjunto del estado pero ese primer punto de nuestra iniciativa habla del modelo republicano y habla de cómo tiene que ser una jefatura del estado

reflejado en ese texto haciendo referencia para la república a la que ustedes aspiran al igual que otros grupos el mío pues se ve reflejado en la república a la que nosotros aspiramos

los que tienen que ver con la rendición de cuentas de la casa real

pues hay bastantes grupos que están de acuerdo con ellos creo que nadie ha hecho referencia a la cuestión del sociómetro que planteábamos que a mí

el ofrecimiento y el tono del señor pastor de que se pueda votar por puntos nuestra iniciativa y espero que tal vez

pueda aprobarse algo porque sí que es cierto que en un debate como este sobre el tema republicano que para nosotros es muy importante hubiera sido

que estoy convencido es mayoritariamente republicano y creo que así además se desprende de lo que han dicho los diferentes grupos pues no saliera

el señor sémper dice que nosotros no dotamos de contenido a nuestra propuesta republicana nosotros tenemos nuestra propuesta republicana plena de contenido que lógicamente no se parece nada a la propuesta política del partido popular aunque se hicieran republicanos estoy convencido

yo ya dije que traía aquí una iniciativa de principios republicanos una iniciativa lo suficientemente amplia para ser respaldada mayoritariamente por este parlamento si nosotros traemos aquí una iniciativa de contenidos profundos es muy difícil llegar a acuerdos amplios los principios de igualdad legalidad fraternidad pueden ser interpretados y llevados a la práctica de diferentes maneras seguramente lo que usted entiende por igualdad legalidad y fraternidad es diferente

yo considero que actualmente en el estado español no hay esa igualdad y esa fraternidad republicana a la que yo aspiro y a la que nuestro grupo aspira y una de las cuestiones concretita es esa que hay un jefe del estado

de este país unos valores sí herederos de la revolución francesa recuerde que lo primero que hicieron fue cortarle la cabeza al rey tenga cuidado

he hecho referencia a que hay cientos de miles de republicanas y republicanos actuales hoy en día igual de herederos de esos valores de igualdad legalidad y fraternidad y muchos de ellos igual de herederos

de pasionaria y de santiago carrillo también entre otra las posiciones políticas evolucionan entre otras cosas han hecho ustedes referencia a mi partido al partido comunista es un partido marxista

o en relación a la realidad concreta que también evoluciona y por lo tanto pues en ocasiones no conviene mantener una posición si

a eso se le llama dogmatismo que es algo que nosotros no somos y que mi amplia coalición

por lo tanto no era una cuestión de satisfacción personal es que hay mucha gente en este país y sobre todo

joven también los veteranos pero la gente joven que cada vez más

un modelo plenamente democrático y eso pasa por la república pasa por la república o por las repúblicas amaitzen joan pero eso pasa por el modelo republicado sin lugar a dudas

agradezco al señor pastor el ofrecimiento y les exonero a que su partido avance en las posiciones republicanas más decididamente creo si no me equivoco que en su último congreso las juventudes hicieron un intento con una

creo que nos encontramos muchas y muchos muchas gracias eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

no tenía intención de intervenir pero en fin lo haremos brevemente primero quiero agradecerle el tono de la intervención al señor hernández porque creo que en esos términos hay que plantearlo pero desde luego también quiero decir a todos

ni ustedes ni nadie y eso lo quiero dejar encima de la mesa aprovechando que tenemos dentro de tres días la celebración

seguimos celebrando como los primeros porque nos parece un hito histórico importantísimo

donde se proclamó por primera vez en cualquier caso de la misma forma que seguimos defendiendo la legitimidad republicana y los valores republicanos también defendemos los grandes consensos

a la democracia y estamos orgullosos de hacerlo aquí algunos hablan de otras cosas de repúblicas con k y de otra serie de historias que tienen poco que ver con esto

nosotros tenemos plena legitimidad histórica y política

y por eso queremos volver a decir aquí y reivindicar la inmensa generosidad política que socialistas y comunistas especialmente tuvieron para que este país pudiera tener un estado democrático que ahora algunos lo difaman pero en fin el estado es democrático por mucho que a algunos no les gusten algunas decisiones que se toman

que refleja un poco cómo vemos los socialistas cómo hemos visto esta situación yo

minero socialista republicano que durante la época de la dictadura celebraba todos los catorce de abril como no se podía hacer de otra forma no iba a trabajar a la mina

en la puerta de su casa y siempre recordaba la república y aquella lucha que mantuvieron pero fue el primero

que hicieron posible e incluida la monarquía que hicieron posible la constitución para acabar

es el que nosotros queremos seguir reivindicando todavía hoy eskerrik asko pastor jauna

en primer lugar en respuesta al partido popular el señor sémper ha acuñado hoy un nuevo término la monarquía republicana que es un oxímoron

no tiene cabida en las enciclopedias de ciencia política mire señor sémper usted

han alabado en repetidas ocasiones las bondades y el buen hacer del monarca su gran preparación y

si tan ejemplar se le presenta a felipe sexto estoy seguro de que

ganaría de calle unas elecciones a la jefatura del estado unas elecciones que se convocasen a la jefatura del estado solo le tenemos que animar a presentarse

contrastaría con las de algunos de sus antecesores que no han llevado precisamente una vida muy ejemplar la historia de españa está trufada de monarcas incompetentes de monarcas irresponsables

y usted lo sabe qué habría que hacer en estos casos es decir

monarca fallezca u obligarle a retirarse

en ese caso cómo se dirime esa cuestión a nuestro juicio la monarquía lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir es un anacronismo histórico y democrático y no la mezcle con los derechos históricos

que de alguna manera porque a qué derecho se le atribuye

por el que se instauraban las monarquías en su momento

con lo que está usted comentando vuelvo a repetir que para nosotros es un anacronismo histórico

y dijo aquello de que en el futuro solo habrá cinco reyes en el mundo los cuatro de la baraja y la reina de inglaterra con lo cual

pues ese momento creo que no está muy lejos de acontecer a lo dicho por elkarrekin podemos

un par de cosas y también a eh bildu por supuesto en parte

sin más un poco por la abolición de la monarquía en españa es un argumento simplista que requiere de algún matiz a nuestro juicio a nosotros una república española

tampoco se lo digo ahora no nos arregla gran cosa para nosotros se han de recoger nuestra relación con el estado su encaje en su caso constitucional y el marco jurídico político creemos que es un poco

la equiparación entre las bondades de esa democracia federal y la república federal y los derechos territoriales democráticos de todos incluidos los vascos por supuesto

sea monarquía o república el estado español ha de dar respuesta a las aspiraciones de las diferentes naciones que conforman

por su reconocimiento en el caso vasco esta reivindicación tiene un hecho diferencial amparado en los derechos históricos

que provienen de los viejos fueros y en la voluntad también

eskerrik asko presidente andrea para ir terminando este apasionante debate

señor hernández no es legalidad igualdad y fraternidad sino que es

igualdad y fraternidad valores que sí están recogidos afortunadamente y consagrados en nuestra constitución valores que sí son obviamente republicanos pero que se han extendido y han sido interiorizados por las democracias modernas independientemente del sistema y del modelo

para convivir y para dotarse de normas y para representar al estado pero esos valores son los que han impregnado obviamente occidente después

al menos las sociedades que así se llaman modernas y por eso nuestra constitución insisto porque esto me parece relevante sanciona que españa se constituye en un estado social y democrático de derecho se podrá decir otra cosa

desmienten a quien quiera derrumbar esta idea que está anclada en nuestros principios constitucionales y que además inspiran

por mucho que algunos se empeñen en desmontarlo y en decir lo contrario y no es cierto señor hernández que un modelo plenamente democrático le cito pase por la república no es cierto es radicalmente falso o al menos

porque existen numerosos ejemplos que desmienten lo que usted

es que el reino unido no es plenamente democrático no lo es noruega suecia no lo es holanda de verdad que viene usted a esta tribuna a defender esto

para justificar que no le hace falta a estas alturas de la película señor urizar

animadversión no solo a la corona sino a lo que

no les representa este parlamento porque yo tengo algo de memoria a este parlamento le llamaban el parlamento vascongado porque no representa a la gran euskal herria de esto nos acordamos todos

no les representa el lehendakari porque es el lehendakari de una euskadi cercenada cómo les va a representar el rey

y para terminar con el señor latxaga yo he intentado reflexionar en voz alta

el mismo argumento de los valores republicanos es el que he querido explicarle a usted porque creo que nos podemos salir un poco

que nuestro sistema es una monarquía parlamentaria republicana en ese sentido

reproduciendo como papagayos ningún manual de derecho o de política estamos parlamentando

como tampoco se puede aplicar el derecho de autodeterminación al país vasco y ustedes ahora ya menos ahora ya son estos señores pero también han defendido el derecho de autodeterminación cuando no tiene

ninguna cabida en euskadi y claro que es lo mismo porque su argumento anacronismo

vale para los derechos históricos de hecho es el argumento que utilizan aquellas formaciones políticas que atacan a nuestro régimen foral su anacronismo

es que esto no es hoy día anacrónico es que

para nuestras instituciones forales para el origen mismo de lo que justifica que hoy estemos aquí

los derechos forales dios sabino arana que vino siglos después o fue un monarca español

quién sancionó los derechos forales y quién

a nuestros derechos históricos más que la monarquía española pero de qué está usted hablando cuando habla de anacronismo de verdad que esos son los argumentos pues me parecen

xahutzea ante la petición razonable además desde mi punto de vista de tomar las riendas este gobierno ofrece a este paso cuarenta años más de lo mismo parapetados en que es necesario llegar a acuerdos ahí estamos absolutamente de acuerdo lo que no podemos aceptar

teniendo que pedir permiso a madrid incluso para establecer cosas que siempre les digo

teniendo que pedir permiso para contratar más profesores o más médicas ese modelo

ya dije hace tres semanas que el altar de la unidad española exige cada vez mayores sacrificios y ahora vemos a pedro sánchez utilizar aquel lema de no es no

que llevó al propio sánchez a la secretaría general de su partido después de haber sido defenestrado

para decir que no habrá independencia que no habrá derecho de autodeterminación que no es no creo que no era lo que apoyaron sus militantes lo que por encima de los poderes establecidos de los poderes tácticos españoles le auparon a la secretaría general fíjese creo que no en vez de ser un estadista capaz de atender a lo que está pasando en europa

la capacidad democrática de preguntar a la ciudadanía dice que no su respuesta es que no

egiten ez badugu atzera egingo dugulako atzera egiten ari garelako cuando digo que debemos actuar como país lo digo porque a mí

cuando el gobierno sánchez le anuncia que transferirá las competencias de tráfico

a mí como ciudadana vasca incluso como miembro y parte del primer partido de la oposición

prometiéndoles con cuarenta años de retraso cuarenta años que se dicen pronto

menores que iban a llegar en noviembre que se iban a materializar en marzo pero que parece que se materializarán hoy o mañana o pasado

porque no les queda otro remedio me duele el mercadeo merkadeoa eta beste behin ere baieztatzeak

nosotros queremos que a este país le vaya muy bien que le vaya estupendamente que le vaya muy muy bien nosotras y nosotros somos

algunas y algunos con nietos y nietas en este país que queremos lo mejor para ellas que queremos lo mejor para las personas que eligen este país para vivir con nosotros y con nosotras queremos lo mejor para todos los hombres y mujeres que viven en este país por eso nos desconcierta

la actitud sea la de decir que en los próximos años pues bueno seguiremos con la misma estrategia eso no puede ser

hitz egiteko nola ere además que así lo reconoce la propia proponente es decir que no es que

y lo mismo creo que ocurre hoy con esta iniciativa creo que lo de menos

o la reforma laboral son coartadas para lo que de verdad

que es el primer punto el de la relación de igual a igual con el estado y el derecho a decidir

que obviamente se explica por el contexto electoral que es algo absolutamente legítimo pero que creo que sinceramente tanto en el enfoque de fondo

a tres obviamente basado en la propuesta original de euskal herria bildu ya que la transacción

las preocupaciones de la mayoría de la ciudadanía vasca la ciudadanía está preocupada por la vivienda por la calidad del empleo por las pensiones

y hoy ustedes obvian las preocupaciones de la mayoría de este país solo las utilizan para hablar una vez de sus preocupaciones

su preocupación parece que empieza a ser más una obsesión y es un tema legítimo pero de ningún modo puede ser el único ni el que condicione lo social

el segundo que una vez más en su obsesión confunde los propios términos del debate territorial

revela sus intenciones su iniciativa se titula literalmente las oportunidades que cierra la situación política en el estado directamente las dan por pérdidas las dan por cerradas y el motivo es muy simple que nunca creyeron que estaban abiertas no lo creyeron porque desde el minuto uno ustedes buscan un marco de confrontación con el estado porque además lo dicen abiertamente y mientras unos estamos tratando de abrir candados de abrir espacios de diálogo como el gobierno central y el gobierno catalán

ustedes anhelaban el marco de confrontación que es donde se sienten cómodos eta hirugarrena da justu hori konfrontazio marko horren

eta dirudienez ez duzue intentziorik hau aldatzeko como decía el tercer es precisamente que ese anhelo de un marco de confrontación con el estado les ha llevado en los últimos meses a cometer

tumbaron los presupuestos generales del estado más sociales de la historia reciente llevándose por delante el bienestar de amplios sectores sociales

y lo hizo porque condicionó unos presupuestos sociales a una cuestión que aunque legítima nada tiene que ver con unos presupuestos como es el derecho de decidir de cataluña

y hoy su moción debería partir de la autocrítica con su propia estrategia en los últimos meses en vez de intentar darnos lecciones al resto que estuvimos y peleándonos para que efectivamente estuviéramos ante un hito social histórico el de la mayor subida de la historia del salario mínimo el de la subida de las pensiones

el del apoyo a los autónomos el de la igualdad entre mujeres y hombres de tantas y tantas medidas que elkarrekin podemos arrancó con sudor a sánchez en el congreso

tocó convalidar en forma de decreto ley parte de esos avances sociales que se habían impedido por la irresponsabilidad

y ahí estuvo una vez más el partido nacionalista vasco jugando un papel parecido pero también diferente al de ustedes antzekoa

mira que el juego que al que ha jugado el pnv es parecido al que juegan ustedes a condicionar por lo territorial un error muy grave porque ahí estuvo el señor esteban amagando con tumbar el decreto para bajar los precios de alquiler de vivienda porque no se transfería una autopista esa es la agenda del pnv en madrid mercadear con el derecho de autogobierno de todos los vascos poniendo el riesgo los derechos sociales como el de la vivienda

sacan pecho es que sacan pecho de haber amagado con tumbar un decreto que puede beneficiar al alquiler de cientos de miles de familias

más respeto al autogobierno de toda la ciudadanía vasca más respeto al derecho de autogobierno de toda la ciudadanía vasca

ustedes se creen que el autogobierno de nuestro pueblo es patrimonio exclusivo de ustedes y flaco favor hacen a nuestro autogobierno convirtiéndolo permanentemente

para investiduras y para aprobación de presupuestos flaco favor cada vez que lo hacen nuestro derecho el de todos los vascos a que se respete y se cumpla de forma integral el estatuto de gernika

por suerte hay otras maneras de defender y de entender los intereses de euskadi

porque tenemos una visión amplia de las necesidades y los retos de este país

de madrid y es lo que hemos recogido en nuestra enmienda a la totalidad

priorizar lo social la reforma laboral las pensiones

las personas refugiadas promover acuerdos entre diferentes para poner

y dialogante en lo territorial y plantar cara plantar cara a los discursos de odio de la extrema derecha y de la derecha y plantar cara al fascismo claramente

con vox hace falta un cordón sanitario sin duda y no permitir también que vuelva el partido popular de la corrupción y de la involución por supuesto pero también hace falta que ustedes el psoe no vuelva a las andadas de siempre a las que dicta felipe gonzález a las que dicta susana díaz o rodríguez ibarra a las que dicta el ibex treinta y cinco

que dejen de plantearse como opción pactar con la derecha que representa ciudadanos que ustedes digan que con rivera y su ciento cincuenta y cinco permanente no hay nada que hablar

no hay pacto posible que con rivera y su centralismo y españolismo rancio no hay coalición de gobierno y en realidad es que el mejor antídoto que tiene la ciudadanía vasca para cortar de raíz

en este caso es apoyar a unidos podemos cuanto más fuerte

más difícil tendrán ustedes volver la mirada a ciudadanos

a los señores del pnv que no descartan ninguna opción de acuerdo después del veintiocho de abril independientemente

ya le vimos sostener sin escrúpulos a un corrupto de derechas llamado rajoy ya le vimos sostener al pp mientras aplicaba el ciento cincuenta y cinco

por eso hoy todo lo que ustedes digan no tendrá credibilidad porque cada vez que ustedes negaban sus pactos con el pp más fuerte
era su apoyo a rajoy eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

en primer lugar agradecerle al señor martínez sus consejitos que sabe que yo los escucho todos con mucha atención no luego yo tengo una sensación extraña cuando subo a esta tribuna hoy es como si estuviera

oyendo hablar exactamente de las mismas cosas poniendo como excusa los derechos sociales para en realidad hablar de lo que ambos al pnv y a bildu les interesa que es del tema de independencia la autodeterminación es el ropaje con que se disfraza

ahora sí quiero hacerle un agradecimiento expreso agradecimiento de verdad

porque he visto que usted es capaz de averiguar por su propia sapiencia qué es lo que piensan los votantes y los militantes socialistas respecto a lo que hace pedro sánchez

para que le haga la interpretación de lo que pensamos los socialistas pero creo que se equivocaría mucho con la respuesta bien en cualquier caso

no empezara la campaña electoral una casualidad venimos como si en quince días la ciudadanía vasca no fuera a votar

porque se vote a quien se vote eso es lo que se va a decidir eso es lo que de verdad se va a decidir venimos como si bildu no quisiera que este debate sea la previa del acto de apertura que van a celebrar esta noche en que es consecuencia que las derechas y ustedes entre otros

para impedir que prosperasen los presupuestos más sociales en mucho tiempo y que también les iban a venir bien a los vascos aunque luego se quisieran arropar de un ropaje de credibilidad y solvencia

el gobierno sánchez algo que por cierto molestó bastante al partido nacionalista vasco pero lo que se ha buscado es otra cosa no es otra cosa que un último acto de precampaña esto es en realidad el debate de hoy

de iniciativa en la que se utilizan los más vistosos ropajes sociales para disfrazar lo único que de verdad les interesa que es eso que llaman derecho a decidir y que es la exigencia de independencia todo lo demás son adornos florales

eso y no otra cosa es lo que está en discusión una discusión en la que los socialistas por supuesto vamos a participar aunque como en tantas ocasiones la izquierda abertzale nos quiera presentar como invitados de piedra

pero como si no fuéramos vascos como si fuéramos de otra categoría distinta

fuéramos pues meros espectadores de esa cansina disputa a lo pimpinela que mantienen ustedes y el pnv para ver quién es más nacionalista que quién y a nosotros nos convierte en una especie de espectadores de esa tragicomedia que ustedes escenifican en esta tribuna cada cierto tiempo pero participamos

de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra para determinar en qué sentido quieren que se tomen las medidas que tanto nos afectan las que se toman desde el gobierno de españa y todos los partidos que representamos en esta cámara todos

queremos tener la mayor representación en las cortes para influir allí en todo lo que tenga repercusión aquí pero tenemos diferentes urgencias muy diferentes eso está claro

en la interpelación que da origen a esta moción dijo que lo que le urgía era irse de españa ese era el sustrato y supongo que por eso va a pedir el voto para el congreso y para el senado porque se quiere ir de españa usted sabrá también se alarmó por la deuda pública

cuando esta se destina a atender necesidades sociales el problema es que haya esas necesidades y el rigor a la hora de gestionar la economía que es algo que parece que ustedes no quieren pero en fin sus urgencias son las que son irse de españa y nuestras urgencias señora iriarte

y de eso van estas elecciones no de las suyas sino de los ciudadanos vascos y como nosotros somos también ciudadanos vascos aunque usted nos relegue a una segunda división pues en fin a los ciudadanos vascos les urge que más del medio millón de pensionistas vascos

quieren que se blinde un sistema público que actualice sus ingresos y saben dónde quiere que se blinde en la constitución ahí es donde piden que se blinde

y que no se rompa la caja que les garantiza el cobro de su pensión

la mitad de la población es que se desarrollen políticas de igualdad efectiva que rompan todas las brechas que se mantienen

ni la independencia de euskadi lo que le urge a la decenas de miles de trabajadores precarizados en euskadi es que se actualice el salario mínimo

no que se les condene a la miseria y por supuesto que se les prometa como solución el oasis independentista

es que termine la humillación de quienes desprecian los restos abandonados en cunetas y exaltan al dictador

el oasis independentista lo que le urge a toda la ciudadanía vasca sin excepción es que pueda preservar el espacio de convivencia que conseguimos levantar a través del estatuto

ni por los que defienden otra cosa muy distinta eso es lo que urge

y recuperar el diálogo como el mejor instrumento de acción política que hemos sabido encontrar para resolver los problemas y solventar

como la vasca porque claro que tenemos diferencia y lo que para usted es un problema lo que para bildu significa

pues para los socialistas es un inmenso valor lo que lo es que usted y yo y el pp y el pnv y podemos estemos en esta tribuna defendiendo lo que queremos y acordando cuando es posible

reconocer la pluralidad y encauzarla como en cualquier democracia dentro de las reglas que pactamos

verá que hay gente en euskadi que cuando vote va a votar cosas que a usted no le gustan y serán votos vascos tan legítimos

de lo que se trata a partir de esta noche que de cada cual sepamos qué va a explicar a la ciudadanía

tiene que votar y para qué van a servir sus votos eso es lo importante ustedes parece que les van a explicar que sirven para ir a madrid a quejarse por tener que ir a madrid ese va a ser el argumento

lo vamos a volcar en defender los intereses de las mujeres vascas de los pensionistas vascos

de los jóvenes vascos del autogobierno y de la convivencia para todos que nuestro futuro se dirime también entre un gobierno de involución o uno de progreso

no vamos a engañar a nadie no vamos a decir que nos apoyen para ir a madrid

y no vamos a atizar banderas ni a cavar trincheras

hace casi un año con el cambio de gobierno el proyecto lo truncaron entre otros ustedes

y los independentismos jugaron juntos para cargarse un gobierno de progreso y estamos convencidos de que ahora los vascos no van a ir a las urnas con el desprecio hacia españa

creemos y lo van a ver ustedes que van a ir con bastante más conciencia de lo que está en juego

el parlamento vasco manifiesta que para poder asentar una sincera cultura de respeto mutuo y lealtad interinstitucional

y los acuerdos alcanzados y así evitando que se haga uso político de dichos incumplimientos

de incumplimientos y siempre se ha desarrollado el autogobierno en muchas fases

en la aprobación de los presupuestos en los momentos de investidura por qué porque estaba todo el desarrollo atascado

su esfuerzo su presencia en el desarrollo de esas materias que estaban que tenían que ser no hoy solo reconocidas sino cumplidas y materializadas por ley

evitar todo eso hace falta una nueva relación una imprescindible nueva relación un nuevo modelo relacional con el estado basado en la igualdad la bilateralidad y el pacto con la incorporación del consiguiente régimen o sistema de garantías

es novedoso no hemos discutido cuántas veces en la ponencia de autogobierno y aquí pero esa es la historia del estatuto ahora me quiere decir el señor

modelo territorial es que a mí cuando uno asiste

a la manifestación que se ha celebrado hace dos semanas en la que desde determinadas comunidades se denuncia

se manifiestan en madrid de qué modelo territorial estamos hablando cuando un estado está configurando un modelo

y solo madrid y está despoblando todo lo demás ni qué decir en el ámbito competencial

cuando están vaciando su propia españa están despoblando como decía recientemente cayo lara y está grabada su referencia es mala la independencia para los españoles para los andaluces

quién paga la independencia la independencia de cataluña o de euskadi como dice cómo pagamos el per dice cómo pagamos el per

y los vascos cómo pagamos el per cuando una españa una españa como a la que no solamente las instituciones europeas también el fmi le está diciendo oye

público estructural más alto de europa dos tienen un endeudamiento en torno al billón

tienes el sistema de pensiones a la deriva de qué modelo estamos hablando

que resulta intelectualmente cansino repetir permanentemente y asistir permanentemente a los mismos argumentos en bucle en esta especie de noria

para oír una y otra vez los mismos argumentos y las mismas entelequias hoy ya además convertidas en mitin electoral porque claro los tiempos corren para esto y ustedes han venido señora incluso la propia construcción de su discurso denota un mitin electoral

derecho porque el reglamento de esta cámara se lo permite pero no deja de ser agotador intelectualmente

no condiciona que le podamos responder claro

o a pesar de que ustedes hayan conseguido un acuerdo con el partido nacionalista vasco uno más en una materia como esta consigue usted su objetivo principal que es picar al señor egibar en esta leche en esta pelea

en esta pelea que ustedes tienen a ver quién es más nacionalista quién es más puro y quién ha hecho mejor

encajado en la construcción de la gran euskal herria el señor egibar sale también a la tribuna y le dice que no yo más todavía

esta es una historia ya conocida lo sabemos los argumentos se repiten y llevamos años en una ponencia de autogobierno reflexionando sobre qué somos sobre nuestro ombligo y sobre qué queremos ser años

oyendo sus reflexiones sobre el derecho a decidir y la grandeza y la pureza

no contentos con eso también seguimos en este pleno y tenemos que asistir sin quererlo a un mitin de eh bildu y del partido nacionalista vasco

o donde ustedes quieran y lo digo

con cansancio intelectual señor egibar desde el respeto créame que me merece su figura

y yo creo que ya está bien de verdad tenemos infinidad de problemas en esta sociedad que abordar y que resolver tenemos capacidad para hacerlo competencias

la semana pasada le preguntábamos al lehendakari sobre la ley de aportaciones qué pasa que no se renueva la ley de aportaciones

que priva de oportunidades a las diputaciones forales y a los ayuntamientos qué sucede con este centralismo

y que prohíbe recursos y veta los recursos a las diputaciones forales y a los ayuntamientos por qué no se pone en marcha qué sucede con una ley de educación que a todas luces se ha quedado obsoleta y que no responde a las necesidades del siglo veintiuno

y chicas cómo es posible que todos los datos internacionales todos los parámetros a los que se somete a nuestro nivel educativo suspenso y resulta que llevamos más de la mitad de la legislatura y este gobierno con capacidades plenas para legislar y este parlamento con capacidades plenas para legislar

que podamos debatir y que podamos ofrecer a la sociedad vasca para afrontar el futuro con más garantías y de esto no se habla y ustedes se niegan permanentemente con el raca raca del derecho a decidir y si tenemos el ombligo más grande o más pequeño que nuestro vecino y esto a ustedes les resultará muy satisfactorio y probablemente

de que esto tiene una fecha de caducidad y que este chollo se les va

luego lo pronuncio peor si quieren tan carca y tan viejo que a veces uno se tiene que pellizcar euskal herria está sometida

usted no tiene ninguna pinta de estar sometida señora iriarte créame se lo digo con toda

se lo digo con toda la prudencia que cabe esta tecnología bélica propia de una nostalgia franquista que es la que

hasta el presente del siglo veintiuno resulta agotadora intelectualmente madrid nos quiere sumisos

esto es a lo que tenemos que asistir en las puertas del año dos mil veinte

en pleno siglo veintiuno con los inmensos retos que tenemos que afrontar y que somos incapaces culpa fundamentalmente de ustedes porque son el poder establecido en esta tierra son incapaces de impulsar el envejecimiento de la población

la fuga de talentos la incapacidad de atraer también talento sobre estas cosas en este parlamento no se habla

y sobre que la señora iriarte se siente sometida y es sumisa y no vive en un pueblo libre bueno no sé si usted es sumisa lo ha dicho esto es

y para qué hemos estado señor egibar tanto tiempo tantos años

por qué están unos supuestos expertos debatiendo sobre las bases que ustedes han aprobado en solitario

pastor estoy completamente de acuerdo con usted aquí hay rangos

y otros que somos vascos o no dependerá de lo que nos permitan porque las bases que ustedes han aprobado empiezan a diseñar y dibujar esa euskal herria soñada bajando el contenido ya a la concreción

o auténticas o no esto de nacionales y ciudadanos en una verdadera innovación

en pleno siglo veintiuno en una sociedad democrática y moderna como es la nuestra y esto es al final el terreno de juego señor martínez el que nos plantean los nacionalistas

de una manera absolutamente irresponsable porque esto ya no es una cuestión de matices no es una cuestión de si uno cojea un poco más hacia la derecha o hacia la izquierda si tiene un modelo social o tiene otro es romper las reglas del juego

que son aquellos que emanan sin duda antes hablábamos de la revolución francesa pero que emanan de los textos constitucionales del bloque de constitucionalidad que igual que españa u otros países de nuestro entorno se han dotado de ellos lo que representa la unión europea

que vamos a renovar su parlamento en las próximas elecciones aquí la gente preocupada que vienen vox que vienen los salvini claro que estamos preocupados por el ascenso de salvini por el ascenso

y estos qué representan

de concordia de entendimiento de supresión de fronteras no están anclados en los principios

porque todavía tengo derecho a hablar muchas gracias eskerrik asko sémper jauna erantzunen txandara

risas y sonrisas a mí me parece un tema muy serio

muy serio lo primero que tengo que lamentar es su discurso y yo entiendo que usted

lo que no puedo entender es que mi derecho a que mi proyecto político se pueda materializar no lo defiendan democracia debe ser escuchar a la ciudadanía lo ha dicho antes la señora llanos pues escuchen a la ciudadanía mire si se cumplen las cuentas señor sémper ustedes están encaminados a una terrible crisis con un presidente que sin duda será cuestionado por haber cosechado los peores

y desde luego la corrupción tendrá un peso muy importante en ello pero desde luego también tendrá mucho peso cómo han gestionado la crisis territorial decía rajoy que antes se rompería cataluña que españa y cataluña sigue intacta y su partido está a punto de estallar en mil pedazos señor pastor

desde luego nosotros somos las vascas y vascos de segunda categoría que no podemos ya ya no absolutamente así los que no podemos llevar adelante nuestros

nuestros anhelos políticos y ustedes además señor pastor saben perfectamente saben perfectamente que el inmovilismo del sistema español es irresponsable que es absolutamente irresponsable que ningún sistema democrático puede permanecer impasible

de por ejemplo cataluña o euskal herria en este caso no se siente vinculada a españa y ese es el caso y ustedes saben que no pueden mirar a otro lado y están mirando a otro lado

ningún matiz con el partido popular y con ciudadanos y lo están haciendo y tienen dos opciones tienen la opción de mirar a europa y de mirar a países de nuestro entorno y de preguntar a la ciudadanía o tienen la opción de seguir utilizando la misma receta que han utilizado hasta ahora mismo

no tenían herramientas suficientes para construir un estado y casi lo tienen y aquí sí teníamos herramientas suficientes para construir un estado y creo yo que no se quiso suficiente y creo que entre otras cosas una de las razones de la decisión entre el partido nacionalista vasco y euzko alkartasuna fue esa y ahora treinta y cinco año más tarde estamos donde estamos

una empezando por el señor egibar porque es la más breve me interesa la historia no pretendía

y de noria argumental y temática y que uno pensaba y tenía cierta esperanza en el que la ponencia autogobierno nos liberara al menos

a ustedes los que estamos en esa ponencia no pues a circunscribir ahí este tipo de debates

aunque es verdad señor egibar que a mí me está resultando por todo el mundo es conocido el juego que tradicionalmente ha hecho el partido nacionalista vasco pero no deja de sorprenderme muchas cosas como por ejemplo que en este programa electoral que tengo en el programa electoral que ustedes presentan en estas próximas elecciones no aparezca ni el derecho a decidir ni el nuevo estatus y entonces claro resulta que

volverá intuyo que volverá cuando ustedes consideren que es oportuno y es

y bildu antes ha habido una batalla a ver quién es más nacionalista o quién más independentista y ahora ha habido una que es a ver quién democratiza

claro y el señor martínez decía no es verdad no hemos conseguido democratizar españa en cinco años

a democratizar del sistema algo sí les ha venido bien el sistema este que ustedes quieren subvertir

provee que un muchacho de vallecas pueda acabar viviendo en una villa con piscina el sistema provee y usted es un buen ejemplo

no es que no hayan conseguido democratizar españa es que no han ganado las elecciones

factor a tener en cuenta para poder influir y para

tiene que ganar la gente le tiene que votar mayoritariamente tiene que conformar gobiernos y es verdad

es cierto ustedes están en puertas es posible no es descabellado de llegar a un acuerdo con pedro sánchez y gobernar españa es verdad

pero a día de hoy no lo han podido hacer no porque españa no sea un país democrático señor martínez es que no han ganado ustedes y en democracia insisto para ganar

que usted se lamente de que no han conseguido democratizar españa de verdad

señora iriarte mire la única sí bueno lo ha dicho en repetidas ocasiones

y que españa no es un país democrático o no es un estado democrático bueno pero

eh bildu la izquierda abertzale hable de que españa

democrático cuando ustedes han aceptado el ordenamiento jurídico español

a través del cumplimiento de las normas que el ordenamiento jurídico les impone y que si hubieran tenido

incluso demuestra que el estado es implacable y que el estado incluso con quienes como ustedes representan su tradición política representa la historia más aparte de la historia más negra reciente de euskadi estén ahí sentados en igualdad de condiciones que otros

y representamos utilizando el plural mayestático la parte de la reciente historia reciente de euskadi más noble

incluso de la suya dice mucho de este sistema del que usted

porque ahora colaborarán y ahora participarán y ahora aprueban decretos leyes y ahora muestran su disponibilidad a colaborar en la gobernabilidad de españa y esto tendrá sus consecuencias si no lo conseguimos impedir o los ciudadanos con su voto mejor dicho no lo consiguen impedir

yo le voy a pedir humildad humildad le voy a pedir que cuando hablen de democracia

demuestren un poco más de sensibilidad y de humildad porque esa bancada lo que representa políticamente esa bancada no ha hecho

ni por la democracia ni por euskadi desde luego no ha hecho mucho menos algo cercano

y en virtud de eso yo le puedo decir con total tranquilidad que el partido popular vasco ha hecho más por euskadi de lo que ustedes nunca serán capaces de hacer muchas gracias